cobardía para tomar decisiones autónomas que puedan estar sometidas a un juicio crítico

que no puede superar incapacidad para reconocer que en el equilibrio está la virtud ni todo ni nada falta de equilibrio de realismo y de valentía

sabiendo desde el principio que no se moverían de donde siempre han estado los problemas no se solucionan mirando desde la barrera

bale gobernuari da galdera este no que ustedes al gobierno

es un no a la posibilidad de destinar más de ciento cuarenta y dos millónes a políticas sociales y a políticas de empleo y un no a poder ayudar a los colectivos más vulnerables como las mujeres los jóvenes las personas en desempleo de larga duración a las personas pensionistas

qué es lo que ha pasado y a partir de ahí ni un solo minuto más a lamernos las heridas haremos todo lo que podamos para seguir trabajando por la sociedad vasca

ayer le escuchábamos decir que se podrán hacer algunas correcciones al presupuesto pero que tienen algunos límites y que no podrán hacerse todas las correcciones de ahí la pregunta que desde nuestro grupo parlamentario le formulamos cuáles son las expectativas que el gobierno tiene

al ejercicio dos mil diecinueve desde una perspectiva presupuestaria

antes de responderle me gustaría agradecer públicamente el trabajo de muchas personas estos últimos meses comienzo por dar las gracias a todas las personas de la edición de presupuestos

estuviera perfectamente diseñado a los grupos que sustentan al gobierno

al equipo de negociación del departamento por su dedicación y por supuesto al lehendakari por la confianza que ha depositado en todos nosotros y nosotras eskerrik asko no ha podido ser eh bildu ha dejado pasar el tren

en madrid como todos ustedes saben y jamás repito jamás he vivido un proceso de negociación

porque esa es la palabra que gana entre todas las que se me ocurren decepción y lo peor no es que hayan engañado al gobierno lo imperdonable es que han engañado a miles de personas generando falsas expectativas faltando a la verdad

el gobierno vasco cuenta con los mecanismos necesarios jurídicos y presupuestarios para seguir garantizando el bienestar a la ciudadanía vasca e impulsando el desarrollo económico de euskadi

de corrección importantes pero no vamos a negar que también limitaciones el gobierno va a seguir trabajando como lo sabemos hacer con objetivos claros

comprometidos y viables jugando en el campo que nos corresponde con responsabilidad como toca a un gobierno en los próximos días analizaremos cómo tratar de minorar

a esta realidad con el mismo esfuerzo y compromiso por el bien común desde el rigor y la honestidad los aspectos más destacables del régimen de prórrogas son

por sus importes a finales del treinta y uno de diciembre se pueden incrementar las retribuciones del personal en un porcentaje máximo y provisional idéntico al del año anterior

a incrementar como máximo por el mismo importe que el autorizado el año anterior se pueden prestar garantías como máximo por el mismo importe del año anterior durante el periodo de prórroga el régimen de transferencias habilitaciones y modificaciones presupuestarias es el mismo

y las aportaciones serán las fijadas por el consejo vasco de finanzas públicas sobra decir que desde el departamento que dirijo trataremos de establecer las medidas oportunas para que el resto de departamentos puedan desarrollar el mayor número posible de proyectos de los que estaban incluidos en el presupuesto del año dos mil diecinueve además

para ser complementadas como saben necesitamos contar con el apoyo de algún grupo y en ello también

la burbuja la comodidad de quien no se equivoca porque no toma decisiones han vuelto a perder ustedes una oportunidad de contribuir a que este país garantice los servicios sociales y la ayuda a quien más lo necesita también las personas pensionistas estamos hablando de competencias y ustedes supieron

no dispone de la competencia no dispone de la competencia de las pensiones el mejor ejemplo es que este miércoles este parlamento ha vuelto a reivindicar esta competencia para euskadi con el voto a favor de su grupo parlamentario

en todo caso el gobierno ha demostrado la disposición a mejorar los ingresos de las personas pensionistas que más lo necesitan

que sí es nuestra competencia la renta de garantía de ingresos la vía de las ayudas por prestaciones ustedes con su inmovilismo obstaculizan en la práctica

cien euros más al mes en dos años eso han conseguido frustrar esa oportunidad realista y posible para ustedes parece que negociar es sinónimo

las propuestas prorrogadas y dar respuesta a las necesidades reales de toda la sociedad y arbitrar las medidas

que son un compromiso no con un partido político sino con la sociedad les sugiero la decisión de contribuir con rigor y con realismo y responsabilidad a que este país

apostaba claramente por planes privados de pensiones complementarias y pedía

parece que lo hacen a propósito que los pensionistas piden pensiones dignas pues pactaban ustedes con el pp

no a las epsv bueno pues ahí va el señor rementeria y el señor aspiazu

y es que lo que se busca con estos mensajes está muy claro es hacer calar entre la ciudadanía

en sí mismo para avanzar en su privatización su gobierno y su partido el pnv es evidente

ayer acabáramos votando a favor de lo público lo que luego refleja son los hechos desde luego ustedes mucho menos confían en un sistema público de pensiones

hemos escuchado es un sistema que cínicamente llaman mixto o público privado

pero que en realidad esconde una cosa muy sencilla un sistema público con pensiones mínimas de subsistencia miseria y que quien pueda y haya tenido mejores trabajos

a una sociedad profundamente insolidaria más injusta y más desigual y frente a este modelo lo que nosotros hacemos es contraponer

que sea la prioridad de las instituciones que sea bien financiado con cotizaciones e impuestos justos a los que más tienen y a los que más ganan un sistema que está

ustedes es evidente que no irán pero mañana estaremos otro día más junto a las personas pensionistas de este país estaremos con los sindicatos vascos que se han adherido a la convocatoria todos se han adherido estaremos en las manifestaciones convocadas con un lema claro

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor martínez yo respeto que venga usted a aquí a hacer todos los anuncios

es que cuando le digo que usted no dice verdad que de alguna vez en algún momento usted se ajuste a la realidad de las cosas que se dicen y a la realidad de los hechos

y lo demostramos con hechos mínimo vital en términos de equidad en la renta de garantía de ingresos complementos en la renta de garantía de ingresos a las personas más necesitadas también las pensionistas demanda de la gestión del régimen económico de la seguridad social para una mejor garantía de las pensiones públicas futuras mucho antes de que ustedes vinieran a este parlamento con representación parlamentaria mire las

complementaria de pensiones es un sistema que funciona correctamente en euskadi desde los años ochenta

siempre en un marco de acuerdo entre la empresa y la representación sindical señor martínez funciona siempre como complemento sin cuestionar en ningún caso el sistema público funciona correctamente en muchas empresas y grupos empresariales

siempre de acuerdo con los sindicatos y quiero recordarle señor martínez que su grupo ha reclamado la recuperación de los acuerdos de itzarri su grupo ustedes proponen este sistema complementario y no por ello cuestionan el sistema de pensiones públicas pues nosotros igual señor martínez igual que ustedes

y vamos a seguir trabajando primero en un cambio de valores nos corresponde hacer pedagogía y trasladar que las epsv

social importante esta labor debemos hacerla con los agentes económicos y sociales y también con los grupos parlamentarios valor social importante de las epsv que usted reclama para los funcionarios públicos señor martínez

también hacer pedagogía en un diseño adecuado de los incentivos siempre en colaboración con las juntas generales con el objetivo de lograr que la fiscalidad sea más eficaz rentas medias y bajas mire señor martínez compartimos el objetivo de garantía del sistema de las pensiones públicas le sugiero que analicen con rigor y seriedad la prioridad de avanzar también

complementaria porque se trata de extender al conjunto de la sociedad el mismo modelo que usted defiende para las personas que trabajan en la función pública

es un programa que tiene objetivos concretos y que ha estado siempre enfocado a reforzar las políticas de alquiler promovidas por los diferentes gobiernos no podemos negar que es un programa que en los últimos tiempos está teniendo

a la espera en su momento del pronunciamiento por parte del tribunal constitucional en lo que refería a una serie de artículos relativos a la ley de vivienda que estaban encaminados a toda la definición de lo que era

vivienda vacía nosotros nos pronunciamos al respeto de reforzar y seguir apoyando al gobierno en

de que el derecho subjetivo a tener una vivienda es ya una realidad a la espera del decreto correspondiente se debe combinar la construcción de nuevas viviendas de protección oficial

de un parque de viviendas privadas que estén destinadas también al alquiler hay que captar viviendas deshabitadas para poderlas destinar a dicho fin alokabide está haciendo un buen trabajo

y sin duda alguna se está recabando un buen número y es lógico y además es acertado que desde alokabide

y es lógico porque atendiendo a una cuestión de sentido común si única y exclusivamente nos fuéramos a promover vivienda en alquiler por parte de este gobierno sería además de mucho más caro

complicado primero por una cuestión de plazos hay que tener en cuenta que la construcción de viviendas no se hace de un día para otro y por otro lado por una cuestión

construirlas que promover políticas de alquiler a través de este tipo de programas ustedes tienen datos y así lo indican es decir promover una vivienda social desde luego desde el propio gobierno

euros cosa que evidentemente es muchísimo más barato si atendemos a los objetivos y si atendemos a las condiciones a través de las cuales se ponen en marcha o se sacan

viviendas a través del programa bizigune teniendo en cuenta

euros anuales por tanto habida cuenta de la relevancia que tiene este tipo de programas habida cuenta de los objetivos que se han marcado este gobierno

de políticas de vivienda en alquiler me gustaría saber qué grado de cumplimiento ha habido en cuanto a los objetivos que se marcó este gobierno
en relación al programa bizigune durante este año eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

en los presupuestos para este año dos mil dieciocho nos marcamos una meta ambiciosa

cuando en el pasado diciembre contábamos con

como sabe se viene produciendo un alza continuada en el precio de los alquileres sobre todo en las capitales lo que implica un gran hándicap para bizigune que tiene un tope de renta de seiscientos euros mensuales y si a esto se suma

y una oferta de alquiler muy reducida la dificultad para captar

es evidente pero a pesar de todo el programa está funcionando

de un precio razonable ofrecemos a los propietarios seguridad en el cobro de la renta y sobre todo la garantía de que van a recuperar el piso en las mismas condiciones en la que lo entregaron hemos hecho este año una campaña de publicidad muy intensa y ha tenido efecto

a finales del mes pasado el número de viviendas de bizigune gestionadas por alokabide

lo que ya es un récord absoluto en este programa creo que alguna apuesta he ganado para que tenga un elemento de comparación la cifra máxima anterior se alcanzó en dos mil trece con un total de cinco mil ciento setenta y cuatro viviendas pero las circunstancias no eran ni de lejos tan adversas como ahora y además la renta máxima ofrecida por bizigune

es decir la cantidad que hemos recuperado este año dos mil dieciocho

haber estado hasta dos mil dieciséis en cuatrocientos cincuenta euros como máximo

en el año dos mil diecisiete esperamos que al final de diciembre

estaremos por tanto cerca del objetivo que nos marcamos para este año

hasta finales de noviembre no solo se habían mantenido el número de pisos del programa sino que se había incrementado en cuatrocientos ochenta y uno un once coma cinco por ciento

y lo que es significativo es que la tasa de continuidad el porcentaje de renovación de los contratos vencidos al cabo de los seis años

lo que demuestra la confianza creciente de los propietarios en este programa programa que queremos seguir ampliando contamos ya con pisos del programa bizigune en ciento treinta municipios de euskadi setenta municipios en bizkaia cincuenta y uno en gipuzkoa y diecinueve en araba y estamos impulsando como sabe usted

para captar viviendas libres que son propiedad de los ayuntamientos en definitiva

de impulsar de cara a tener posibilidades reales de ofrecer a la ciudadanía

de impulsar el derecho subjetivo

el parque de alquiler que gestiona alokabide ha alcanzado ya otro hito superar

le confieso que estoy seriamente preocupado y quiero trasladarle hoy mi preocupación a usted por la responsabilidad que le incumbe como lehendakari a usted y a su gobierno

a los hechos gravísimos que ocurrieron hace muy pocos días en el campus de álava en la universidad un joven fue acorralado por un grupo de

por expresar sus ideas por manifestar su disidencia frente al ambiente en el que tiene que vivir cada día en la facultad quiero decirle que los hechos son muy graves ocurren aquí cerca quizás queremos minimizar todo

pero no es un hecho aislado lo que es un hecho aislado es que haya una persona que tenga la valentía de plantar cara

en la universidad lo que es un hecho aislado es que nuestros jóvenes puedan acudir fíjese ir a la universidad que es

que es la vivencia más importante que tenemos en nuestra época formativa acudir a ese espacio público y ver que es un hecho aislado poder manifestar la libertad de expresión en plenitud poder

eso pasa en el país vasco y no es un hecho aislado qué había pasado antes en la universidad

la guardia civil entró en el mes de junio en la universidad vasca entró en aquella facultad en el mismo campus de álava en una operación ordenada por la audiencia nacional

desde allí se organizaban los actos de homenaje a criminales de eta qué

pidió explicaciones al delegado del gobierno porque la guardia civil hubiera entrado allí a defender la libertad de todos qué es lo que está pasando ahora si se dan una vuelta por el campus de álava

es evidente que el ambiente algo ha mejorado pero no parece que demasiado para el ejercicio de las libertades por parte de los estudiantes usted lo verá lleno de carteles de pancartas

de apoyo a los mensajes de la izquierda abertzale esas pancartas dicen este es nuestro espacio

pasar por ahí no podrá pensar de una manera distinta qué es lo que ha pasado esta semana esta semana en la universidad esos grupos

en el que quieren educar a los jóvenes todo esto que ocurre es muy grave yo le tengo que pedir exigir no

sino que ponga en marcha una política que efectivamente garantice que la libertad se va ensanchando y es plena

qué pedagogía hacemos nosotros desde este parlamento cuando con sus votos y los de eh bildu

qué estamos diciendo cuando pactamos aquí un texto que habla de que los vascos tienen dos categorías nacionales y ciudadanos qué estamos diciendo fíjese como se ha quedado después de esta aventura de acuerdos con la izquierda abertzale empantanado en el callejón sin salida donde le llevaban ellos

no pasa nada con eso eso ya se arreglará pero qué hacemos ahora señor lehendakari qué hacemos ahora yo he intentado rebajar tensión

y para hacer un proyecto de verdad de futuro para nuestros jóvenes en euskadi haga una reflexión estas navidades eskerrik asko

legebiltzar buru anderea señor alonso aprovechando que el batán pasar por gasteiz yo reflexiono

en las dos primeras preguntas de esta sesión parlamentaria en relación a los presupuestos algo de lo que ustedes se auto descartaron señor alonso ustedes se auto descartaron por razones extra presupuestarias mire hace dos semanas un joven estudiante fue agredido por un grupo de intolerantes por el mero hecho de defender sus ideas y reitero la valoración que tuve ocasión de transmitir en respuesta pública expreso a este joven en nombre del gobierno y la sociedad vasca

inadmisible de violencia e intolerancia estamos ante una agresión que tiene que ver con la incapacidad de aceptar la pluralidad que nos constituye como sociedad democrática

hoy ninguna corriente política justifica ni legitima una agresión de este tipo señor alonso ninguna

pues mire según el último sociómetro el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en euskadi si sitúa en el punto más alto

es evidente que el estado de las libertades en euskadi es diferente y mejor las instituciones responden

y continuará investigando la universidad se ha movilizado señor alonso la justicia actuará la representación política e institucional manifiesta una condena absoluta la inmensa mayoría de nuestra sociedad defiende la libertad de expresión de quien piensa de manera diferente

no pone en riesgo el estado de nuestras libertades porque estamos de acuerdo en prevenir en condenar y en perseguir este tipo de hechos y efectivamente la agresión ha sido grave ahora bien esta agresión

todo lo contrario solo concita rechazo y no tiene opción alguna de prender en nuestra sociedad beraz lehen unetik

para responder cuando estos hechos se producen detener y poner a sus autores ante la justicia trabajamos promoviendo

respeto y tolerancia la reflexión crítica sobre el pasado es fundamental para la deslegitimación del uso de la violencia

obtenga una respuesta unitaria e inequívoca de defensa del pluralismo

estoy seguro señor alonso de que coincidiremos en la necesaria unidad en esta tarea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua

en la crisis de la naval desde hace año y medio nuestro grupo político viene demandándoles un compromiso real

por sestao y por la margen izquierda y viene reclamándoles un papel un liderazgo en la crisis de la naval nuestra oposición ha intentado ser crítica y constructiva

la falta de respuesta de su gobierno nos ha causado una profunda decepción

también ha supuesto una decepción yo diría que histórica para la margen izquierda por lo menos a la altura de la decepción que supuso para la margen izquierda el cierre de altos hornos de bizkaia y el cierre

el cierre de altos hornos se produjo como consecuencia de la crisis del petróleo de los años setenta el cierre de la babcock se produjo como consecuencia de la globalización y de las

noventa el cierre de la naval sin embargo se produce se va a producir por la codicia empresarial por los restos de la codicia

le leo que los actuales dueños de la naval están procesados por administración desleal por uso de información privilegiada por adopción de acuerdos abusivos por actos contra la libre competencia del mercado por delitos de apropiación indebida

y como consecuencia de esta mala gestión de la naval nos enfrentamos al que posiblemente va a ser de la empresa pero este no es un cierre más este es el cierre igualmente este no es un astillero más este es el astillero

este cierre hace que usted como lehendakari la consejera tapia puedan correr

en el cierre de la naval y puede que esto les parezca poco pero todavía pueden mencionar si quieren en la margen izquierda la palabra solchaga a ver a qué suena solchaga lo peor de este cierre a diferencia del de altos hornos y el de la babcock es que este es un cierre evitable

era inevitable que esas empresas cerraran pero no es inevitable que cierre la naval no lo es no es inevitable que cierre una empresa viable que entre dos mil siete y dos mil trece ganó cincuenta millónes de euros no es inevitable porque se debe a una mala gestión empresarial y no es inevitable porque además a día de hoy el sector de la construcción naval en europa está batiendo

tenido ese compromiso con la naval por qué no se ha adoptado este papel activo al contrario lo que hemos tenido ha sido una actitud pasiva de esperar al inversor

habida cuenta de que la naval no es como traspasar una pescadería la naval para articular el traspaso de los dueños de la naval es necesaria una solución muy compleja lo sabe usted lo sabe su consejera tanto desde el punto de vista jurídico como empresarial y el gobierno vasco tenía la capacidad de hacerlo lo ha hecho y lo mismo que esta actitud pasiva es incomprensible esta falta de compromiso que yo diría sangrante de dejar pasar el tiempo antes del concurso había que preparar el concurso durante el concurso no se podía hacer nada porque había concurso y después del concurso llega la liquidación y el cierre sin que hayan hecho nada

el desprecio que ha mostrado su gobierno por la voluntad democrática de esta cámara en esta cámara se aprobó una moción el pasado mes de

y un informe que respaldase la compra de la naval bien en la primera reunión de la mesa tripartita a la reunión con la ministra reyes maroto no acudió la consejera no acudió el viceconsejero no acudió el director no acudió

el quinto escalafón eso no es compromiso con la naval

y en lugar de hacer un informe que respaldase un informe que respaldase la compra han hecho un informe pensado para descartar la compra lo dijo el señor casanova en su lo calificó el señor casanova en su pregunta hace un par de semanas un informe impresentable un informe impresentable

la propia plantilla quien contrate un informe que avale esta compra quien contrate y pague un informe

acerca del papel que ha tenido la plantilla en esta crisis suelen decir ustedes que

los grupos de la oposición lo tenemos muy fácil cuando hacemos los discursos porque tenemos a la grada de nuestro favor

a un empresario con una empresa en dificultades verle en la grada con una camiseta que dijera salven mi empresa a me hubiera gustado a los propietarios de la naval en la manifestación del pasado día uno

diciendo queremos que se salve la naval por qué no están ahí

que se salve la empresa son siempre los trabajadores y las trabajadoras porque quienes los únicos los únicos que buscan el arraigo y el futuro de la naval son la plantilla

como si hay el empresario del año o la emprendedora del mes pero esta plantilla además tiene una circunstancia especial

la fábrica la virtud de esa plantilla

solo por la naval están peleando por todo un pueblo y por toda una comarca por una industria auxiliar y por las dos mil familias que se van a quedar fuera

por lo tanto es incomprensible que ante una naval que está mostrando compromiso papel activo y liderazgo

mostrando todo lo contrario todo lo contrario señor lehendakari le voy a decir una cosa las consecuencias de esta actitud pasiva

es que tarde o temprano la ciudadanía acaba minando su confianza tanto en las instituciones como en la democracia

acaban apareciendo cantamañanas como trump como vox o como el frente nacional diciendo que si la unión europea prohíbe

de adquirir una empresa para salvarla que entonces para qué queremos a la unión europea para qué queremos a los gobiernos

lehendakari que sestao es ahora mismo el detroit vasco es el detroit vasco es una población que ha perdido un tercio de su población del setenta y ocho a aquí es una población que tiene la mitad de renta per cápita

sestao que getxo y ahora mismo en sestao

que está deseando que usted asuma su responsabilidad yo no le estoy interpelando acerca de lo que no han hecho en el futuro le estoy interpelando perdón

para que por favor no deje caer a la naval esté a la altura del reto histórico que le está suponiendo esto

de la naval peleen por la industria de la margen izquierda peleen por nuestras comarcas y peleen por su gente

les pido por favor que miren a la plantilla que miren a la grada y
que se inspiren en ella para seguir adelante gracias eskerrik asko

arazorik gabe señala usted señor becerra en la justificación de su interpelación que

y debo matizarle me va a permitir diciendo que el desarrollo industrial de ezkerraldea y del conjunto del país pasa por muchísimas actividades

más allá de la naval ojalá pudiéramos estar hablando de una naval fuerte activa con trabajo viento en popa permítame la expresión pero seamos realistas y atendamos realmente a lo que existe la actividad de la naval ha estado parada desde el verano de dos mil diecisiete como usted bien sabe

continua creciendo por tanto estamos preocupados sí ocupados también y comprometidos con todos y cada uno de los problemas

de todos y cada uno de ellos y eso está bien está bien que además desde el parlamento una y otra vez estemos hablando una de estas empresas pero además a los representantes públicos nos toca no ser tremendistas no tergiversar y evitar

pero aun así si le parece vamos a centrarnos en la actividad de la margen izquierda de la que usted también estaba hablando del sector naval y de la actividad de la margen izquierda un sector por cierto en el que llevamos tiempo trabajando no solo desde ahora porque de la legislatura pasada nos encontramos con un elemento muy relevante

y ponía en una situación crítica a todo nuestro sector naval por cierto el sector naval privado no voy a decir único pero

y en ese momento empezamos a trabajar con el sector naval no ahora

en el inicio y a todos nos toca asumir nuestra responsabilidad cada uno desde el ámbito en el que se encuentra y usted muy bien decía

y desde la actuación que ha mantenido pero seamos realistas a cada uno lo que le toca y me pregunta si nos vamos o le pregunta al lehendakari si nos vamos a comprometer

en la empresa la naval y la respuesta es solo una y es sí por supuesto pero no porque usted me interpele

añado más asumir responsabilidades nos corresponde a todos

punto de vista y desde sus competencias y a nosotros por supuesto desde lo nuestro es nuestra responsabilidad trabajar con el sector naval

primero en el acompañamiento a un sector que también tiene que hacer un desarrollo tecnológico muy relevante

para introducir buques y servicios innovadores en la internacionalización del mismo porque usted bien decía el sector en europa está boyante y también lo está en euskadi también lo está en general en euskadi y en el conjunto del estado trabajamos de la mano de todo ese sector que está aglutinado en el foro marítimo vasco porque no es solamente la industria naval en sí misma sino

referencia y a la que hay que poner también en la última tendencia tecnológica y además ofrecer servicios de consultoría que les permita financiar todos esos buques que tienen que poner en funcionamiento que no es baladí y usted lo sabe bien también y ahí tenemos el acompañamiento también de

y el gobierno vasco junto con los gobiernos de galicia asturias donde existen también astilleros privados

bueno es un elemento en el que tenemos una trayectoria no nacemos ayer y tenemos una trayectoria pero ni siquiera nacemos en el dos mil trece

por tanto vamos a continuar en ese sentido trabajando con el sector naval en su conjunto es un clúster asociados en un clúster en el foro marítimo vasco donde además trabajando con el sector energético también están ampliando y diversificando sus actividades y usted lo sabe bien por tanto el resultado de la recuperación o el resultado del trabajo ha sido la recuperación de la actividad en euskadi

o estemos en una situación comprometida como usted lo quiera ver como consecuencia de que no existen contratos todo lo contrario

por múltiples circunstancias en las que no voy a entrar porque como usted bien dice creo que

a futuro creo además que desde los grupos de la comisión de desarrollo económico ustedes han tenido ocasión de poder visitar cómo se encuentra cómo trabaja cuáles son las tecnologías que están aplicando por tanto es un sector que está boyante que está trabajando y que lo está haciendo bien ahora bien en la naval que es una de esas empresas relevante sin duda pero una de esas empresas

en este parlamento de análisis de lo que había que hacer en esas zonas desfavorecidas en especial en la margen izquierda y también

tres años de esa ponencia bueno ha habido dos elementos dos encargos importantes al gobierno uno de ellos era el plan de choque de zonas desfavorecidas que se presentó que se presentó un plan de choque que quizá el nombre no sea lo más adecuado es un plan de acción a corto plazo durante

y el dos mil diecinueve mientras se elabora un plan estratégico que también se ha puesto en marcha

dieciocho actuaciones y sesenta y cuatro millónes de euros que estaban previstos la mayoría de ellos en el diecinueve pero que comenzaron en el dieciocho y a los que sin duda trataremos de dar cauce de la mejor manera posible para que puedan llevarse a cabo por tanto actuaciones importantes para

para abogar por la formación por una vivienda digna y por muchas otras actuaciones que de forma conjunta hay que llevar en la margen izquierda centrémonos

hubo otra mesa tripartita que lo importante en ese caso es qué se pone sobre la mesa y qué hay que trabajar y hay dos elementos que son clave

en primer lugar para dar continuidad a esta empresa hace falta sí o sí uno o varios inversores privados que permitan después

sí o sí y podemos debatir si el gobierno puede entrar en mayoría o en minoría tenemos informes suficientes que avalen que no podemos pasar del cincuenta por ciento pero es un debate aparte

en este momento ya no son ni administradores a la propiedad previa y en esa fase nos encontramos y al mismo tiempo poner en marcha otras dos actuaciones de las que también ayer se habló que se ejecuten de la mejor manera posible las garantías de esos trabajadores que tienen garantía de vuelva a la sepi de una forma flexible que nos permita

cuando la actividad en la naval vuelva a ser una realidad y para aquellas personas que se quedan sin esa garantía porque también las hay qué planificación vamos a poner en marcha

una continuidad a futuro esos son los dos aspectos más relevantes en estos momentos es la única forma de dar continuidad a esa empresa y el gobierno desde luego junto con

plenamente convencido y actuando cien por ciento posibilidad sea una realidad en este momento buscando esos inversores atrayéndolos y tratando de

articular esa propuesta que permita que la naval sea una realidad a futuro una realidad con carga de trabajo con garantía de continuidad y que permita que el sector auxiliar con el que también se está trabajando desde el foro marítimo vasco pueda tener

de aquí en adelante esas son las líneas de actuación y no cabe otra actuación y desde nuestra responsabilidad cien por ciento en todas y cada una de las líneas de acción

no me sorprende pero me apena me apena porque da cuenta realmente de cuál es la responsabilidad de este gobierno respecto a la naval que usted haya dedicado seis de los diez minutos a hablar de la industria naval en lugar de la naval

porque es evidente que ustedes están a otra cosa que estén a otra cosa es su legítimo derecho pero en la margen izquierda están a la naval en la margen izquierda están a la naval y en sestao están a la naval

no han hecho nada señora tapia no han hecho nada en este año lo único que han hecho es faltar a la verdad

que les había mandado un escrito una carta la comisión europea advirtiéndoles sobre la entrada en la naval no se la mandaron a ustedes se la mandó al gobierno de españa

entrar en la naval no se ha prohibido no hay un dictamen de la comisión europea sobre la naval dijeron después que había limitaciones porque la naval ya había recibido ayudas no hay ninguna limitación para que la naval reciba ayudas como consecuencias de haber sido de la sepi

se puede entrar el capital público y dijeron que no podía por más de cincuenta por ciento y hoy dice que sí que se puede discutir si puede ser más

hoy año y medio después sabemos efectivamente sabemos porque hay un informe

experto en derecho mercantil y de la competencia que dice que el problema no es la participación mayoritaria de capital público en la naval y lo tienen que reconocer muy a su pesar es una auténtica pena esto es una auténtica pena cómo han tenido que ir rectificando su postura por el empuje de la plantilla y por el empuje de la oposición

lo que sí pueden hacer es adquirir los activos de la draga los pueden poner a disposición de navantia para convencer al armador para que entre ahí pueden hacerlo

a través de cualquier empresa pública o fondo público por ejemplo socade

a una empresa público privada pueden hacerlo también pueden recuperar contratos perdidos por la naval para hacer un plan de viabilidad e incluso pueden ir de la mano del ministerio

porque por ejemplo los astilleros franceses de cruceros no dan a basto con los pedidos que tienen y ya el gobierno de españa está previendo poder hacerlos

no han hecho ninguna y esto es un autentica pena y a mí lo que me sorprende es que encima

plan de choque para toda la comarca tiene usted razón el nombre no le hace justicia el nombre se lo puso un periódico plan de poco choque plan de poco choque eso es el plan que ustedes han aprobado

y en este plan lo único que hacen es un compendio de partidas ya existente

la principal es una partida para la variante sur ferroviaria

y salen por bilbao sin tener ninguna actividad industrial a la que dedicarse allí lo que buscan es doblegar

y hacerles repartidores de paquetes de amazon que es lo único que les va a quedar en el futuro y me apena enormemente me apena enormemente que a esta interpelación que yo les he hecho una vez más de buena fe

de seguir de intentar desbloquear la situación de intentar sumarse al esfuerzo modélico que está haciendo la plantilla

ustedes lo único que hagan sea seguir leyendo su libro como si no pasase nada se lo vuelvo a decir una vez más

no dan la respuesta estamos abriendo la puerta al totalitarismo que sí o sí va a poner en solfa a la democracia cuando no es capaz de responder a los retos que tienen pendientes

le hace pasar a la historia por la puerta grande se lo aseguro eskerrik asko becerra jauna

se toman decisiones en el consejo de gobierno y que la responsabilidad que

por tanto responsabilidad en este y en todos los temas la máxima y al máximo nivel en segundo lugar estamos a otra cosa no estamos a todas

esta cosa esta cosa y el tema del gobierno es que

solucionar los problemas de la mejor manera posible ese es nuestro objetivo y en la margen izquierda están a la naval y a todos los problemas de todos y cada uno de los municipios porque son más que uno y hay muchos problemas diferentes a los que usted dice que no damos respuesta y que no hacemos más que poner sobre la mesa la variante sur

analícese usted todo el documento y además de las partidas ya existentes hay sesenta y cuatro millónes extras sesenta y cuatro en un año no son seiscientos cuarenta es cierto pero son sesenta y cuatro millónes extra para la implantación de nuevas empresas para la generación de empleo para la puesta en marcha de un nuevo parque tecnológico infinidad de actuaciones en vivienda y demás y no diga que no

o no se lo ha leído usted analícelo y verá que existe todo eso

me habla de que estamos tergiversando y faltando a la realidad

tan tozuda usted analice lo que se dice lo que dijimos y observará que hemos sido absolutamente coherentes en todo lo que se dijo que la primera vez que se habló de que el gobierno podía tomar esa participación y estaba dispuesto a hacerlo lo dijo el lehendakari

en septiembre de dos mil diecisiete usted mírelo mírelo porque se lo digo millónes de veces y está ahí primera vez que se dijo y primera vez como consecuencia de la cual

la comisión europea sí es cierto pero la comisión europea es lo que tiene se pone en contacto con los estados y todavía no somos estado entonces es verdad

con el ministerio con madrid y desde el ministerio se nos remite esa solicitud de información a la que tenemos que dar respuesta eso es así no tenemos ningún problema en decirlo lo dijimos desde el principio

informes casualidad el que hace el gobierno es de parte pero el que usted tiene en la mano no debe ser de parte no bueno pues hay más informes hay más informes de gabinetes

de una institución donde participamos gobiernos y sector privado que dice exactamente lo siguiente

precio rentabilidad entre otros sería posible que una entidad pública participara en el capital social de la nueva empresa estamos haciendo un informe exacto para la naval

y para facilitar la acreditación de que la inversión de la entidad pública se ha realizado en condiciones de mercado sería conveniente considerar los siguientes aspectos tres en concreto uno la entidad pública debería participar en un porcentaje o inferior al asumido por el inversor privado dos las condiciones económicas de la inversión principalmente aportación de capital y participación en dividendos

tres los derechos políticos de la entidad pública en la nueva empresa deberían ser proporcionales a su participación en el capital social y en esos términos

de la mano de un inversor privado que por cierto tenemos que recordar siempre tiene que querer que estemos con él o con ellos participaremos esas son las condiciones gobierno del estado diputación foral de bizkaia y gobierno vasco bajo esas premisas sí pero

tiene que haber un inversor privado con un proyecto que garantice el futuro y dos el inversor o inversores privados necesitamos que quieran que vayan con ellos por tanto sí y máximo compromiso máximo nivel sin problemas

las trabajadoras de limpieza de comisarías y oficinas judiciales y centros de menores de gipuzkoa están en huelga indefinida desde el pasado diecinueve de septiembre la huelga

llegando a un acuerdo en los convenios de aplicación nos gustaría saber qué medidas va a poner en marcha para erradicar la brecha salarial en este ámbito mila esker eskerrik asko

salarial directa por razón de género segunda medida mediación la dirección de trabajo y seguridad social del gobierno ha estado permanentemente informada de este conflicto laboral el diecinueve de diciembre es decir la semana próxima las partes implicadas empresa y representación sindical han sido convocadas a una reunión para avanzar en una solución y tercera medida respuesta estructural el consejo de gobierno aprobó el veintisiete de noviembre la estrategia y los planes operativos para reducir la brecha salarial en euskadi eskerrik asko

eskerrik asko antes de nada quiero expresar nuestro apoyo desde elkarrekin podemos a las trabajadoras que se encuentran en lucha

siguen en huelga con el único objetivo de erradicar la brecha salarial en el servicio de limpieza de las comisarías

por otro lado nos parece importante señalar que los departamentos de trabajo y justicia y de seguridad del gobierno vasco no han querido reunirse con los sindicatos convocantes asumiendo

es que hasta la fecha la principal preocupación de dichos departamentos se ha fijado en aumentar los servicios mínimos y permitir que se mantenga la limpieza sustituyendo ilegalmente a trabajadoras en huelga un departamento de trabajo y justicia

es juez y parte en este asunto hay que explicar que en el sector de la limpieza las diferencias salariales entre hombres y mujeres pueden llegar en algunos casos

y territorios lo que supone un treinta y cinco por ciento menos de salario esta desigualdad salarial constituye un grave problema social

en el injusto reparto de la renta y en muchos casos en las políticas presupuestarias de recortes y licitaciones a la baja aprovechando la coyuntura no resolverlo lo convierte también en un problema político precisamente una de las cuestiones

que provocaron la huelga del pasado ocho de marzo y es importante decir que el sector de la limpieza externalizado dependiente de las administraciones es un ejemplo evidente

masculinizado como es la limpieza pública viaria más el ochenta por ciento de los trabajadores son hombres y por el otro las subcontratas de limpieza

que está completamente feminizado donde más del noventa y cinco por ciento de las trabajadoras son mujeres de esta manera la brecha salarial en la limpieza de comisarías

al siete por ciento una discriminación salarial de género

con el dinero de todas y de todos en algunas subcontratas dependientes de la administración se consiguieron en años anteriores procesos de equiparación salarial

tenemos el ejemplo podemos seguirlo las trabajadoras que limpian las comisarías y juzgados de gipuzkoa llevan ochenta y siete días para conseguir el mismo objetivo

a tiempo completo suponemos que este gobierno no lo considera excesivo sin embargo el conflicto no se ha solucionado en concreto el departamento de seguridad está elaborando ahora mismo los pliegos de condiciones para la licitación del servicio de limpieza en las comisarías es una buena oportunidad para resolver al menos una parte de este agravio y justicia tanto les cuesta incluir cláusulas sociales

porque las leyes lo permiten y es una cuestión de voluntad política

en euskadi sin embargo en los ámbitos donde tiene responsabilidad y competencia

sino todo lo contrario están tratando de evitar que esta huelga se lleve a cabo para mantener esa injusticia y esta discriminación e insisten en impulsar políticas de igualdad pero en ningún caso

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora garcía va viene va viene va viene

a lo estructural bien yo le he explicado cómo tenemos la primera medida de inspección la segunda mediación la tercera la respuesta estructural

consta ninguna denuncia de discriminación salarial directa por razón de género señora garcía la segunda

el diecinueve de diciembre le reitero las partes implicadas empresa y representación sindical han sido convocadas a una reunión para avanzar en una solución y pasemos a lo estructural hemos realizado un diagnóstico de la situación y evolución de la brecha salarial hemos realizado un contraste con personas expertas del ámbito académico asociaciones de mujeres cabecee todo cuanto quiera señora pero esta es la evidencia hemos estado con organismos e instituciones

y de la ciudadanía y el resultado es una estrategia y un plan operativo que entra en vigor el uno de enero este trabajo da respuesta al requerimiento de este parlamento al requerimiento de este parlamento vasco y lo hemos presentado también en la mesa de diálogo social y el consejo de relaciones laborales por lo tanto actuamos y vamos a seguir actuando el problema es estructural la segregación horizontal deriva a las mujeres a trabajos

por lo general de peores condiciones y la estrategia se plantea entre otras cuestiones para dar la vuelta a esta realidad la realidad a la que usted apela

y nos ocupan las cuestiones más concretas con el concepto de trabajo de igual valor le insto a que reflexione usted también sobre el trabajo de igual valor

definir identificar esos trabajos de igual valor actuamos el plan operativo tiene cuatro ejes de actuación veinte directrices sesenta medidas concretas

en dos mil diecinueve y dos mil veinte para avanzar en la reducción de la brecha salarial primer eje reducir la desigualdad salario hora a través por ejemplo

en los convenios colectivos y acuerdos de empresa de medidas a favor de la igualdad y la conciliación

educación y sensibilización social con iniciativas con impulsar que los centros incorporen la perspectiva de género en sus acciones cuarto eje sensibilización

plantea cláusulas sociales a las que usted también ha hecho referencia cláusulas sociales para priorizar a las empresas que cuenten con planes o medidas para favorecer la igualdad

le garantizo que el gobierno va a seguir adoptando medidas y trabajando por la erradicación de la discriminación salarial vamos a actuar con determinación con seriedad

las medidas y mejorando cada día este creo que es el camino más eficaz para responder a un objetivo prioritario estructural para el presente y futuro de nuestro país

y espero que en relación a la cuestión concreta el próximo día diecinueve haya una solución

popular referente a las medidas del gobierno para impulsar las energías renovables el gobierno vasco viene elaborando planes energéticos desde la década de los ochenta principalmente motivados por contar el país vasco con un sector industrial

altamente consumidoras de energía energía procedente de combustibles fósiles con una alta dependencia del petróleo en estos sectores

la repercusión que esto suponía para la industria vasca como decía el gobierno vasco desde sus primeros años de andadura y con el ánimo de reducir

por un lado definía políticas de ahorro y eficiencia energética diversificar las fuentes de energía apostando por el gas natural como alternativa al petróleo en la industria y también al sector residencial y comercial y desarrollar las energías renovables

y dotarla de una gobernanza efectiva en términos de planificación control y seguimiento en las sucesivas herramientas que se van desarrollando

se incorporan a estos tres objetivos de ahorro eficiencia y diversificación de fuentes de energía y desarrollo

el análisis de impacto ambiental y el suministro eléctrico sostenible la sostenibilidad del suministro y a estas herramientas que las hemos llamado

las vamos incorporando los porcentajes de cumplimiento que vienen determinados por los compromisos acordados a nivel europeo y también

compromisos marcados y que estamos como comunidad autónoma obligados a cumplir porque así lo aprobamos en la estrategia vasca de cambio climático dos mil cincuenta donde decíamos consumo cero de petróleo para usos energéticos en el año dos mil cincuenta

efecto invernadero en un cuarenta por ciento para el año dos mil treinta y un ochenta por ciento para el año dos mil cincuenta alcanzar en el año dos mil cincuenta un consumo de energía renovable del cuarenta por ciento sobre el consumo

y desvincular totalmente de los combustibles fósiles y emisiones

a través de las energías renovables como único suministro energético

como podemos observar en la comunidad autónoma vasca descargamos nuestros compromisos en cambio climático en una parte muy importante en las energías renovables

nuestra realidad en cuanto a consumo de energía podemos decir que el consumo de gas natural y derivados del petróleo se ha reducido pero sigue representando

total de la comunidad autónoma del país vasco tenemos una tarea

importantísima para cumplir con la estrategia de cambio climático también en el desarrollo y en la implantación de las energías renovables en el país vasco la cuota de renovables alcanza el siete por ciento del consumo final de energía el trece por ciento si incluimos la energía eléctrica renovable importada

en biomasa un sesenta y siete coma ocho por ciento en biocarburantes un quince por ciento en hidroeléctrica un ocho coma seis por ciento en eólica un seis coma nueve por ciento y en solar un uno coma ocho por ciento

dos mil treinta nos hemos marcado como objetivo potenciar el uso de las energías renovables un ciento veintiséis por ciento lo que significaría alcanzar una cuota de renovables

del veintiuno por ciento para el año dos mil treinta señorías señora consejera a pesar de que el desarrollo de las energías renovables

y constituye uno de los tres pilares básicos de la política energética vasca desde el inicio de la autonomía la realidad es que avanzamos muy poco en este campo no alcanzamos ni de lejos los objetivos marcados

lo hemos dicho todos usted señora consejera también lo ha afirmado en esta tribuna el primer parque de

está muy próximo a mi lugar de residencia se puso en marcha en el año dos mil en el dos mil dos se aprobó el plan territorial sectorial de energía eólica

en veintinueve emplazamientos finalmente se propusieron once emplazamientos con una potencia de trescientos setenta y siete megavatios y lo que realmente se ejecutó

fueron los cuatro parques de elgea urkilla oiz y badaia y el miniparque de punta lucero ciento cincuenta y tres megavatios que es lo que tenemos en este momento

esta cámara sin ir más lejos aprobó en el año dos mil nueve por unanimidad suspender la tramitación de los parques previstos

a buscar un amplio consenso interinstitucional y social respecto a la política eólica su ubicación y su evaluación ambiental además se instaba al gobierno vasco a la elaboración del segundo pts

y efectivamente en el año dos mil once se inicia la elaboración de ese segundo plan territorial sectorial a finales del dos mil doce se disponía del documento de avance del pts

ahora en octubre ustedes el eve acaba de adjudicar el contrato para la elaboración de documentos para el inicio de la tramitación del segundo pts eólico de euskadi en tres meses

y señora consejera cuál es el calendario que tienen previsto para que este pts vea la luz no se pueden utilizar o no son válidos

como base de trabajo los documentos el avance que se hizo en el pts en el dos mil doce

los ciclos de vientos creo que están estudiados y también serán válidos en este momento y me gustaría saber si ese documento y ese informe de sostenibilidad pueden ser documentos también a trabajar en este momento

que estamos trabajando en una disposición transitoria se comprometen el gobierno

dice la disposición en el plazo de dos años es decir en la siguiente legislatura si la energía eólica es la energía renovable de mayor potencial de desarrollo en nuestra comunidad autónoma

separados de energías renovables señora consejera según los datos que se recogen en la estrategia dos mil treinta al margen de la energía eólica

pero sería siempre en grupos pequeños escalas pequeñas con placas solares para autoconsumo o poco más eso dice décimos en la estrategia dos mil treinta también habla de la energía hidroeléctrica que no tiene futuro de crecimiento relevante la producción

sí como energía para acondicionamiento térmico de instalaciones y de comercio

terrestre y la fotovoltaica puede parecer que de momento de escaso potencial a medio plazo en euskadi

que parece que no tienen un gran desarrollo tenemos mucha tecnología pero hay que seguir avanzando para que realmente ese coste beneficio y resultados sean óptimos señora consejera tanto usted como el señor viceconsejero de industria han solicitado

lo dijo usted esta primavera el gobierno vasco propone un gran pacto para potenciar la energía eólica decía el señor zarraonandia decía es interés del gobierno vasco impulsar un pacto

que posibilite el desarrollo de las energía renovables la eólica en particular el miércoles vendrá el señor ararteko a esta cámara y nos dirá que él ha descubierto que hace falta un pacto social y le recordaremos que

qué quieren hacer cómo quieren trabajar porque habrá que buscar herramientas son posibles y son compatible dos pts eólicas y renovables

los parques actuales me gustaría saber esas medidas y si tiene otras medidas para impulsar las energías renovables el departamento y el gobierno gracias

le agradezco señora lópez de ocariz ha hecho una revisión de la situación bastante exhaustiva por tanto me voy a ahorrar

todos esos datos sí es cierto y yo creo que tenemos que empezar por considerar que

de que a pesar de todos los esfuerzos nos movemos muy lejos todavía de los objetivos que nos hemos planteado que siendo ambiciosos tendían a ser realistas y aun así ese veintiuno por ciento de consumo de energías renovables o que

queda alejado todavía de los objetivos planteados por la unión europea y aun así

partimos de esa situación compleja en la que nos encontramos porque somos en primer lugar un país que está reconocido además industrialmente como una potencia muy relevante en generación eólica y también en fotovoltaica

un lugar donde industrialmente somos pioneros y sin embargo no somos pionero en la implantación y en la generación y yo creo que ese es el paso que nos queda por dar

se aprobó sin embargo se generaron suficientes problemas como para que no se pudiera desarrollar

hacía referencia a que necesitamos un pacto de país necesitamos un pacto de que aquello que vayamos a decir en un próximo pts en el segundo pts lo podamos después sostener en el tiempo

a ejecución a eso nos referimos con ese pacto de país

de ahondar un poco más en esos ámbitos sí le quiero hacer referencia a algunas actuaciones que estamos llevando a cabo desde el ámbito renovable solamente

no es para generación general sino más para autoconsumo pero sí se está trabajando desde luego en dos proyectos interesantes que pueden ser pioneros de utilización a futuro ganando dimensión tanto en lo que es proyecto de coronación aquí en vitoria gasteiz como en txomin enea en cercanías

estamos evaluando los recursos que existen en este momento en rioja alavesa como consecuencia de todas las podas de las viñas y demás que podamos utilizarlas también como un recurso de biomasa o participando en

en esta legislatura está previsto que podamos hacer inversiones por alrededor de treinta y ocho millónes de euros en esas tres líneas principales

de lo que ya teníamos pero sabiendo que también había suscitado suficientes problemas como para no abordar su puesta en marcha es decir se había redactado

el documento de sostenibilidad pero no se conseguía avanzar más porque no existía ese consenso para poderlo llevar adelante por supuesto vamos a tenerlos en cuenta en qué queremos

en gran dimensión podemos trabajar temas de mini eólica puesto que también tenemos empresas que están dedicadas a ello

y en este caso ya que tenemos también puesta en funcionamiento la instalación bimep en armintza seamos capaces de valorar la posibilidad de que exista

sabemos que eso todavía tiene un desarrollo que tiene que realizarse pero ya está adquiriendo una dimensión suficiente en el mundo como para que también dentro de la elaboración de ese pts eólico consideremos no solamente tierra sino que consideremos también el mar

muy concretas pero sobre todo participamos en proyectos

impulsar diferentes actuaciones y donde existe una propuesta de una dimensión algo mayor que también les utilizaríamos como piloto para poderlo escalar a posteriori en la península de zorrozaurre en los que respecta a la energía oceánica

tenemos que continuar investigando pero no lo dejamos de lado creo que tenemos una plataforma que es la de la única que además estando financiada por la unión europea ha funcionado todos y cada uno de los días entregando potencia a la red entregando energía es una

piloto de experimentación y tenemos que continuar ahondando en ese sentido de tal manera que aquello que se experimente en mutriku pueda después llevarse al mar en bimep y a partir de ahí se pueda hacer un escalado

en esa senda sabemos que es más todavía a nivel de escalado de investigación y escalado industrial pero tenemos que continuar en esa onda y en cuanto a fotovoltaica bueno ya saben ustedes lo comentó el lehendakari también en septiembre

general que también empezamos con una implantación de una cierta dimensión veinticuatro megavatios que van a ser instalados en arasur es decir tenemos instalaciones

escolares universitarias y demás en tejados

muchos otros tipos de instalaciones pero queremos poner en funcionamiento y analizar si es posible hacer instalaciones de mayor dimensión y no solamente en tierra sino analizar

flotantes de fotovoltaica analizar en qué lugares y cómo podría ser llevado a cabo bueno esas son las actuaciones que estamos llevando a cabo en cuanto a energía renovable también somos conscientes de que todo lo que es la eficiencia energética y el ahorro conllevan el poder acumular resultados en cuanto a que la generación de renovables aumente su porcentaje

que se aprobó el decreto de sostenibilidad energética en edificios públicos donde hay tres ámbitos muy relevantes de actuación uno de ellos

instalar placas fotovoltaicas e instalaciones renovables en diferentes

un cuarenta por ciento de los edificios públicos disponga de instalación de energía renovable

actualmente eso también conduce a que podamos colaborar y aumentar la generación

en comisión en ponencia y que va a ser aprobado por esta cámara entiendo que en dos mil diecinueve ahí se recoge

renovables y espero que ustedes también se sumen y esperemos que esta cámara por unanimidad consigamos sacar ese decreto que sabemos que no es lo cien por cien de ambición que podríamos tener en cuanto a energía pero que nos va a ayudar a conseguir algunos de los objetivos que nos hemos propuesto

no vamos a poner en funcionamiento evidentemente un segundo pts eólico y uno de energías renovables lo que pretendemos es que en esas energías renovables además

eólica tanto en tierra como en mar se sumen posibles ubicaciones de instalaciones fotovoltaicas que no sean solamente sobre tejados sobre instalaciones

instalaciones mayores como las que se van a poner en funcionamiento en arasur o las que estamos valorando para instalaciones flotantes eso supone que tengamos que tenerlo definido en ese

nos va a permitir si conseguimos ese consenso que espero que así sea tener la suficiente capacidad de abordar instalaciones no solo eólicas sino también fotovoltaicas que conduzcan a que podamos conseguir los objetivos planteados y que ese veintiuno por ciento que tenemos en la estrategia dos mil treinta pueda ser superado y podamos llegar a los indicadores que se nos están planteando desde europa y también

a ese veintiuno por ciento que tenemos en este momento de consumo y que la generación propia haga que ese consumo sea mayor en generación renovable por tanto utilizaremos lo

será donde pongamos la parte eólica y también la fotovoltaica entendemos que es

con el consenso de esta cámara podamos tener una planificación a largo plazo y conseguir que en ese dos mil cincuenta

tengamos además posibilidad de demostrar que somos capaces de generar en el propio país eskerrik asko eskerrik asko

efectivamente señora consejera no me ha dado tiempo a hablar de lo de la industria

y eólica marina que tenemos en nuestra comunidad autónoma y desde luego que es un referente y creo

en dos mil diecinueve el congreso potente de esta energía será en el país vasco

nos enorgullece el tener esa industria y ese potencial que

aporta a nuestra comunidad autónoma pero estamos en esa paradoja en casa del herrero

de madera entonces señora consejera

de lo que tenemos de las expectativas pero con lo que tenemos y con las expectativas que usted ha citado no vamos a llegar al dos mil cincuenta

del ochenta por ciento de la energía fósil por lo tanto hay que hacer algo más algo más potente y usted lo ha dicho en muchas ocasiones que la energía renovable que nos va a ayudar a alcanzar esos objetivos es la energía eólica sea marina que será pero tendrá que ser terrestre

esta cámara ya acordó por unanimidad en el año dos mil nueve que tiene que haber un acuerdo interinstitucional y social y en esas estamos

tenemos que trabajar y eso sería bueno que nos pongamos plazos objetivos y que esta legislatura podamos conseguir tener las herramientas de documento para afrontar

y el pacto interinstitucional y social porque es básico

que requiere de mucho trabajo y de una planificación y cómo ordenamos eso estamos en una época preelectoral complicada

vamos a planificar vamos a ver cómo lo hacemos yo creo que se puede hacer y eso también es bueno yo creo que estamos

muy pacífico y tranquilo muy pacífico y tranquilo luego alguien se dedicó a encender hogueras

muy dialogada con quien lo iba a implantar y de una manera muy tranquila por lo tanto me gustaría que esta legislatura

tanto las herramientas de documento como el pacto social creo que eso sería importante y sería un logro diez años en esta tesitura me parece que ya

algo tenemos que hacer y ese es el compromiso que yo le pido a usted

tal como usted citaba señora lópez de ocariz precisamente los organizadores de ese congreso windeurope que se va a celebrar en abril entre el dos y el cuatro de abril

yo creo que va a ser un congreso de especial relevancia

esa reflexión paradójica y es la palabra que utilizaban cómo un país donde

esa relevancia internacional además y esa forma de trabajar no es capaz de tener proyectos de demostración suficientes teniendo una comunidad autónoma

no somos capaces de poner en funcionamiento parques eólicos de mayor dimensión a ellos también les llamaba muchísimo la atención y yo creo que

en que ese pacto salido de esta cámara sí pero además requiere otras instituciones requiere diputaciones forales requiere municipios donde se vayan a instalar esos parques eólicos o parques fotovoltaicos y requiere de un consenso social estoy plenamente de acuerdo por tanto en nuestro objetivo y nuestra voluntad es precisamente la aprobación de la ley y establecer

abrir una forma de trabajar en la que el acuerdo interinstitucional y social sean incorporados al mismo tiempo que estemos trabajando

también serán más accesibles y más fáciles de tal manera que podamos tener ese consenso que nos permita que en los diez próximos años quien vaya a esta en esta cámara hablando de este tema pueda decir un parque fotovoltaico y un parque eólico que nos hace generar energía renovable que por cierto al dos mil cincuenta no vamos a llegar con el cien por ciento el objetivo es el dos mil cien

un parque importante y una generación relevante en energías renovables eskerrik asko eskerrik asko

y propone una estrategia que deberá acompañar las vías de descarbonización de la unión europea compatible con los acuerdos de paris sin embargo

no es suficiente para establecer el escenario en la que la unión europea está llamada a desplegar cambios radicales en el camino

bienes y servicios la modernidad de hecho

más allá del imperativo ambiental crucial de detener las emisiones de gases de efecto invernadero unos diez años después de la gran crisis financiera el mundo se está dando cuenta

no se han cumplido y no se pueden cumplir otra promesa fundamental de la modernidad para el mundo como la energía barata para todo el mundo basado en la explotación masiva de fósiles o la movilidad ilimitada para personas y bienes han mostrado claramente su inconsistencia

con los límites de los recursos naturales y con sus enormes externalidades impagadas la economía tal como la conocemos opera de manera materialmente expansiva

esto no es sostenible la alternativa a una estrategia de más de lo mismo

en colapso debe basarse en una reconceptualización fundamental de la estructura y funcionamiento del sistema económico actual jarraitzen du eta amaitzen du el tiempo es escaso y los esfuerzos deben de adecuarse al desafío el cual es inmenso nik uste dut eta oso ondo dago

mediante la inversión en soluciones tecnológicas realistas y la capacitación de los ciudadanos y la armonización de la acción en ámbitos clave de la política industrial

se puede conseguir una transición que sea justa social y climáticamente beraz nik uste dut industriaren gaia hemen sartuta dagoela eta beraiek ere

horrela esaten dute tenemos que hacer un camino hacia una economía climáticamente que exigirá una acción conjunta en siete ámbitos estratégicos nik uste dut

oraintxe hitz egin duguna movilidad limpia segura y conectada beraz

infraestructuras e interconexiones competitivas zer esanik ez kasu honetan energia

bioeconomía y sumideros naturales de carbono captura y almacenamiento de carbono

egin behar duguna dónde tenemos la dificultad que no hemos hecho realmente prácticamente nada en captura y almacenamiento de carbono tenemos una línea de actuación en la que tenemos

esaten digu que hemos demostrado cómo reducir en las emisiones

bueno eso tenemos que trasladarlo a tener una europa próspera y al mismo tiempo que ningún europeo ninguna región se quede atrás pero consigamos que europa sea un espacio a la vez climáticamente neutro beraz nik uste dut

gure ikuspegitik daukagu estrategia de cambio climático

aztertzen anteproyecto de ley vasca de cambio climático hiru horien helburuak ikusten baldin baditugu

con ustedes sobre un problema sin precedentes en nuestra historia con la excepción de prevenir la guerra este es el mayor desafío que nuestro país enfrentará durante nuestras vidas nuestra decisión sobre la energía

este difícil esfuerzo será el equivalente moral de la guerra excepto que uniremos esfuerzos para construir y no para destruir eta hitz egiten du sobre inconvenientes sobre sacrificios

zeren euskal energia erakundearen web orrira joaten zarenean beraiek esaten dute el ente vasco de la energía es un ente

edo nire kanpaina egiten laguntzeko hau da proposamena ente vasco de la energía bihurtzen dugu ente vasco de energías renovables eta

paisaia ikusten dugu hor cuarenta mil hectáreas de pino radiata afectadas por una enfermedad

resultantes de un modelo de producción forestal que hoy más que nunca se pone en duda y que las consecuencias más graves de este problema de este modelo todavía se van a ver y me adelanto a su respuesta señora tapia me dirá usted que tiene un plan

bien pero como principal medida de esta estrategia es la fumigación aérea con óxido cuproso en estos pinares

sino en muchas más hectáreas de monte además a día de hoy

sean eficaces para atajar este problema galdera osa erraza zer egingo du gobernuak hemendik

no tenemos un bosque de monocultivo las frondosas son el cincuenta y tres coma cinco por ciento las coníferas el cuarenta y seis coma cinco por ciento se ha ido diversificando el sector para garantizar dos cosas que tenemos

plantados a los que si hay enfermedades hay que hacer frente y por otra parte un sector industrial importante un sector industrial que desde luego

donde tenemos toda la cadena de valor a partir de ahí una enfermedad importante a la que tenemos que hacer frente sí tenemos que frenar esa propagación y hay diferentes formas de hacerlo otros países lo han hecho

sigo voy a ser sincera no voy a seguir ni siquiera la réplica que tenía preparada porque no me ha contestado yo pensaba que me iba a contestar y la tenía preparada

que es una enfermedad estamos de acuerdo pero que es consecuencia de un modelo no me lo podrá negar estamos ante una situación crítica y lanzar mensajes de que bueno tranquilos esto no es un monocultivo

ni siquiera hay permiso para fumigar pero vuelvo a preguntar en caso de tenerlo

algo tan sencillo vamos a fumigar los pinares pero se va a conseguir arreglar el problema

un debate es necesario que usted no ve un monocultivo vamos a debatirlo

tenemos al ayuntamiento de mutriku que se ha opuesto a fumigar qué pasará si expertos como la academia ciencias de médicas esta misma semana advierte que

para la salud humana en caso de fumigar se les va a escuchar este modelo esta caducado ustelduta dauden bakarrak ez dira pinuak eredua ere ustelduta dago para nosotros este modelo no solamente esta caducado sino que está podrido parecido a un montón de pinos deben ustedes asumirlo además es que es muchísimo más sencillo asumirlo tomar medidas y

hay una diferencia entre iparralde araba y nafarroa con gipuzkoa y bizkaia y yo creo que deberían darle una vuelta y saber el porqué por lo menos

es un monocultivo en eso no vamos a estar de acuerdo hoy este monocultivo es ajeno a una gestión sostenible de los montes con intereses económicos que yo no he dicho terratenientes lo ha dicho usted cada vez más concentrados y alejados del primer sector

que inundará nuestros montes con el peligro que supone para la biodiversidad

por un primer sector que gestione el territorio de manera eficaz sostenible y social incluso en eso sí nos vamos a encontrar eztabaidatu

eskerrik asko presidente andrea señora lópez de arroyabe se ve que le he respondido en la primera lo que usted quería que le respondiera en la segunda

tenemos un sector que industrialmente es potente y en este momento se encuentra en problemas tiene

tiene un problema y necesitamos abordarlo y se puede hacer de diferentes maneras de la forma tradicional utilizando clareos

cómo la agencia europea de protección de plantas dice cómo hacerlo y en qué condiciones está autorizado evidentemente no a toda la masa

a aplicar de la misma forma no va a ser utilizada la fumigación como un tratamiento

vamos a decir generalizado sino en aquellos lugares en los que se necesite con las cantidades perfectamente definidas que son

diluido en agua por pino por tanto perfectamente definidos perfectamente autorizados en los lugares donde no existan acuíferos y demás es un tratamiento

ni plan industrial a partir del once de enero ni plantilla

poco a poco no nos queda nada en particular a usted

señora tapia hemos discutido en ocasiones anteriores sobre el informe que presentó su gobierno

un catálogo de excusas para no intervenir usted creo que tiene un problema aunque los que estamos a favor del máximo compromiso en defensa de la naval creo que tenemos una ventaja

de un informe encargado por un sindicato de la naval que dice cosas distintas

ha venido defendiendo el informe todavía no se ha hecho público pero he obtenido permiso para leerle aunque solo sea una pequeña parte

y yo creo que es muy revelador en determinados supuestos la intervención pública podrá ser superior a la privada siempre que esta la privada tenga un impacto

pero yo creo que esto da un vuelco a la situación usted ha calificado antes este informe como un informe de parte yo entiendo que es un informe de parte

de parte de los que quieren poner excusas para no intervenir

abierto el astillero la cuestión de mantener abierta la naval

e irresponsable si así fuera no me cabe ninguna duda que podemos y el partido socialista hubiera introducido una partida en los presupuestos generales del estado en esa dirección

en diferentes ámbitos la cuestión es de voluntad política y usted que conoce este tema desde hace

por prejuicio ideológico y por reservar a la administración al estado y a lo público un papel autolimitado no está desplegando todo el potencial que tiene para mantener el astillero abierto y esa sí que es su responsabilidad y es cuestión de voluntad política de liderazgo de articular un plan integral efectivamente que puede tener también la participación de inversores privados pero que sí o sí tienen que aparecer porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones

y si no crear el inversor adecuado para que junto con la participación de las instituciones

usted le decía antes al señor becerra que quiere pasar a la historia no creo que el señor becerra pase a la historia por esto por esto igual por otras cosas sí yo tampoco tengo la pretensión de pasar a la historia tengo una intención mucho más humilde

hacer el cien por ciento para que la naval pueda seguir abierta antes mencionaba el señor becerra

ese sí pasó a la historia en la margen izquierda por ser el responsable del desmantelamiento industrial no siga su senda no sea usted precisamente la que pase a la historia por ser la consejera de industria que no hizo lo

señor casanova me ha mezclado dos tipos de intervenciones en esta

a ver estamos de acuerdo en que sí o sí tiene que haber un inversor privado uno o varios

sí o sí porque sigo manteniendo lo que dice nuestro informe y lo que dice otro informe de un despacho internacional como a usted le gusta que se llama hogan lovells un despacho internacional no contratado por mí sino contratado por

que es donde estamos gobiernos y astilleros privados que dice lo que he leído y tampoco lo voy a repetir al señor becerra dice exactamente eso luego la voluntad de este gobierno ha sido siempre

participación sí pero acompañando

del ochenta por ciento que puede decir su informe que dice en determinados supuestos lo que dice nuestro informe es que esos determinados supuestos son los de la naval y

pero dicho esto la implicación del gobierno como usted dice dinero hay

a una pregunta del señor becerra creo recordar en la comisión cuando presentamos los presupuestos cómo lo va a hacer dinero hay instrumentos hay voluntad hay

ese inversor privado que no se construye los inversores privados no se construyen existen se construyen después formatos de inversión privada en el que puede haber una administración pública o no eso es otra cosa se articula el cómo pero el inversor privado per sé tiene que ser alguien que vaya a poder dinero y por supuesto

que creo que es lo más relevante de todo y se nos está olvidando en muchas ocasiones inversor privado sí pero no a cualquier precio ni de cualquier forma tenemos que tener inversores privados

que tenemos que garantizar eso porque el empleo es lo que queremos garantizar y un empleo de calidad

y en eso nos tenemos que implicar no solo en buscar un inversor sino en buscar el inversor que garantice todo eso y a partir de ahí con los instrumentos que tenemos con la capacidad y la voluntad de las diferentes administraciones poder ayudar y colaborar a que eso sea una realidad

es que hay que repetirlo tiene que haber voluntad por parte del inversor privado de querer un acompañamiento público y no siempre ocurre

es eso lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo y en este momento nos encontramos ya

donde hay inversores interesados y donde tenemos que conseguir que esos inversores pongan sobre la mesa

interpelazio bat gai honi buruz zuzentzen diogu gobernuari transcurridos dos años de legislatura dos años de legislatura del gobierno del señor

podemos corroborar que este gobierno el gobierno vasco no ha hecho una apuesta decidida por las políticas de apoyo a las familias vascas y por qué décimos esto decimos esto y realizamos esta afirmación tan contundente que desde luego no es la primera vez que la formulamos porque este gobierno se ha retrasado en la aprobación

el marco necesario para implantar las medidas de apoyo a las familias y también como decía se han incumplido los compromisos que este propio gobierno ha adquirido

no los ejemplos sino los hechos concretos en los que se basa

bi urte baino beranduago la estrategia de apoyo a las familias ya nos decía el señor lehendakari allá por el año dos mil quince que llegaría en breve y esa estrategia

de retraso la inversión plurianual de doscientos millónes de euros que nos anunció el lehendakari a bombo y platillo en un acto pre electoral allá por mayo de dos mil quince

las elecciones que finalmente fueron en se adelantaron pero fueron en septiembre del dos mil dieciséis como todos ustedes recordarán el veinticinco de septiembre

el lehendakari nos anuncia una inversión plurianual de doscientos millónes de euros vinculada a la aprobación de la estrategia y del plan de familia la estrategia llega dos años más tarde

el plan de familia más de tres años tarde por lo tanto ese anuncio obviamente se quedó en el aire

en el año dos mil quince el cuarto plan se aprueba concretamente el diecinueve de junio

también indispensable realizarla antes de traer aquí el cuarto plan de familia que también llegó tarde

a cuanto a las herramientas y los instrumentos constituyen marcos donde se despliegan todas las medidas y actuaciones para apoyar las políticas

a la conciliación es que este gobierno también

el plan que acaba en el dos mil quince el plan que nos hablaba de una convergencia con la unión europea en el año dos mil veinte

a los plazos claramente hablamos también del retraso en la implantación del anuncio que ustedes nos hacen al principio de la legislatura en boca del propio lehendakari y en boca también de la consejera de empleo y políticas sociales cuando nos dijeron que se incrementaban las ayudas por el segundo hijo de dos a tres años es que nos lo hicieron al principio de legislatura pues hay que decir que esa ayuda también por la inacción de este gobierno

a las ayudas por nacimiento por hijos por lo tanto un retraso más un incumplimiento más y las perdedoras como siempre nuevamente las familias vascas eso sí hay que decir

las familias vascas no vieron nada de esta ayuda y eso que fue un anuncio realizado

legealdiaren hasieran eta zure hitza gai honetan argi eta garbi ez duzue bete llega el gran anuncio la gran medida de este gobierno que hay que decir que se va a notar otra vez a ver frustradas las exceptivas de miles de vascos el veintiuno de marzo concretamente

el teleberri correspondiente y en los medios de comunicación de una prestación económica para las excedencias

durante doce semanas en los doce meses posteriores al nacimiento que no coincida en el tiempo con el permiso materno y

el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho pues señorías

este compromiso del gobierno

la propia consejera de empleo y políticas sociales a preguntas de distintos portavoces en esta comisión nos dijo que el decreto que ampara y que da cobertura

se aprobaría allá por otoño del dos mil diecinueve pero señora consejera no está el señor lehendakari ustedes nos están tomando el pelo haciendo anuncios a bombo y platillo sobre medidas que parecen que son estrellas que son muy novedosas que incluso las venden como pioneras

posibilidad de hacerlo y además es que tiene la obligación de hacerlo cuando tenemos un problema estructural un reto demográfico que afrontar las tasas de natalidad más bajas

no solo del resto de españa sino de toda europa con una población envejecida con personas jóvenes que no pueden formar una familia con familias que no pueden tener los hijos que les gustaría tener

señora consejera lo decía al principio de mi intervención es la cuarta interpelación

llevamos dos años de legislatura bi urte daramagu eta lau interpelazio aurkeztu ditu alderdi popularrak gai honi buruz la primera la formulamos en relación a los recortes

el famoso siete por ciento que tanto ustedes se dedicaron a criticar durante el mandato

y desde luego mucha prisa en revertir este recorte no tuvieron lo ha tenido que plasmar el partido popular en enmiendas concretas a los sucesivos presupuestos viendo que este gobierno estaba absolutamente inactivo en relación a la remisión

y la propia estrategia y la plasmación de medidas concretas y efectivas que apoyaran a las familias vascas

realizar una política decidida de apoyo a las familias pero es que

en marzo que no llega en relación a ampliar de dos a tres años la ayuda por el segundo hijo es que ha llegado este verano la aprobación de dicho decreto y usted lo anuncian en el principio de la legislatura casi con dos años de retraso nuevamente y esta medida hay que decir esta medida concreta

el año dos mil catorce quiero decir que ustedes tendrán que reconocer que

manifiestamente mejorable y hoy llega la cuarta interpelación señora consejera es intención de este gobierno viendo el balance en las políticas de apoyo a las familias dar un giro en las políticas de apoyo

que ya de una vez por todas puedan ser realidad y no anuncios grandilocuentes que se quedan en el aire por su falta de liderazgo y de compromiso con las familias vascas

sailburuok legebiltzarkideok egunon guztioi pues sí señora garrido es la cuarta vez que yo vengo a responder por esta misma cuestión y le voy a responder lo mismo que le he respondido las tres veces anteriores o las cuatro veces anteriores que este gobierno sí que está dando un apoyo decidido a las políticas

durante el año dos mil dieciséis que yo tuve el honor de ser nombrada consejera

al principio de legislatura hicimos el anuncio de todas las medidas en concreto en materia de política

y una de ellas es la que usted está diciendo en relación al incremento del cincuenta por ciento de las ayudas a los segundos hijos que hemos puesto en marcha este mismo año dos mil dieciocho como bien usted dice con carácter retroactivo pero usted también sabrá que las cuestiones que desde el ámbito jurídico y legal se tienen que trasladar a los diferentes órganos del gobierno y la tramitación de esos decretos

y dura alrededor de nueve meses un año desde que yo soy consejera últimos del dieciséis a primeros del dieciocho está aprobado ese decreto y las familias vascas el uno de enero de dos mil dieciocho transcurrido únicamente un año han podido ver efectiva

los niños estos segundos hijos han tenido en relación al incremento del cincuenta por ciento por tanto señora garrido es verdad que tenemos muchas cosas que hacer es verdad que ustedes como nosotros tenemos

compromiso y objetivo con las familias pero lo que no es verdad es que nosotros no estemos haciendo nada el año dos mil dieciocho ha sido un año muy importante en esta materia

euskadi es una de las regiones de europa con menores tasas de natalidad y por tanto ante esta situación nosotros sí que hemos atendido y sí que hemos planificado las diferentes iniciativas y la hoja de ruta que tenemos que

situación además esto no es algo exclusivo de la sociedad vasca sino de todas las sociedades avanzadas de la unión europea y usted sabe perfectamente que sí que se están dando pasos y que no solo hacemos anuncios

iniciativas que han sido trabajadas y consensuadas con las asociaciones que se ha visto desde el punto de vista de la igualdad y la brecha salarial cuáles son las mejores iniciativas para evitar revertir esas situaciones

dando pasos pasos firmes para conseguir ese objetivo aprobamos el cuarto plan de familia aprobamos vasco por las familias y por la infancia suscribimos ese pacto por unanimidad de acuerdo a los compromisos claros y concretos

en marzo en esta misma cámara también desarrollamos entre todos los grupos políticos de la cámara un debate monográfico sobre las familias se aprobaron una serie de iniciativas que fueron incorporadas a ese cuarto plan para su mejora

todas las iniciativas que usted bien conoce en la comisión de empleo y políticas sociales ya hemos avanzado mucho en el diseño y en la planificación para poner en marcha políticas que claramente apoyen a las familias vascas pero usted

el interés que pueda tener usted y su partido en cuestiones de familia no es más que el mío y el del mi equipo y del resto del gobierno y nosotros estamos volcados en este asunto el gobierno reconoce

promovemos políticas que faciliten a las personas con responsabilidades familiares y a aquellas otras que quieran construir una familia la realización de ese proyecto vital

intentamos superar las dificultades económicas o laborables que puedan impedirlo y para eso estamos trabajando con los colectivos sociales con la patronal con los sindicatos con el objetivo de poner en marcha realmente políticas efectivas y no solamente políticas de cara a la galería la familias para nosotros es la institución que ha demostrado más capacidad para mantenerse

demográficas la primera ha pasado de ser una familia extensa a ser otra de dimensión más nuclear y la segunda se ha

en los contenidos como en lo que es la propia

y todo ello todo ello ha venido y se ha recogido en ese cuarto plan

y una de ellas tiene que ver con el acceso de las personas con hijos e hijas en situaciones de desempleo algo en lo que tenemos que trabajar

y estamos poniendo proyectos el año pasado fueron tres empresas piloto las que trabajaban en el ámbito de la conciliación y la corresponsabilidad este año ya son treinta el año que viene intentaremos que sean otras treinta con el objetivo de cambiar la cultura señora garrido porque esto no lo hacemos de la noche a la mañana

y creo que lo estamos haciendo complicado otros países que tuvieron este problema empezaron a adoptar medidas en el ámbito de la natalidad después de la segundo guerra mundial como fue francia y transcurridos cuarenta años están viendo los resultados por tanto señora garrido nosotros ya llevamos trabajando como comunidad autónoma y como gobierno en el ámbito de las políticas familiares

universal la única comunidad en el estado que lo hace y por tanto creo que tenemos perfecta credibilidad para poder decir que las familias para nosotros son algo muy relevante y no hacemos anuncios grandilocuentes nosotros hicimos una apuesta

por la excedencia laboral con el objeto de garantizar la cobertura económica de las excedencias para el cónyuge no gestante porque confiamos en esa medida porque creemos que facilita realmente la igualdad porque va a luchar contra la brecha salarial porque nos va a dar igualdad de oportunidades

a los niños que van a tener la posibilidad de compartir con sus padres los dos

durante el primer año de vida una situación que hasta la fecha ninguna comunidad autónoma ni el estado español ha puesto encima de la mesa nosotros estamos trabajando

y también reforzando programas de parentalidad y también creando

un marco donde vayamos a trabajar desde la coordinación tributaria para analizar las posibilidades de gestionar de forma integrada

importantes que tenemos que abordar porque las ayudas a las familias no solo pasa por dar ayudas económicas señora garrido ni por ayudas a la conciliación desde el punto de vista

servicios y esos servicios los estamos dando desde el departamento de educación también se están poniendo en práctica diferentes iniciativas con el objetivo de que las familias que cobren menos de dieciocho mil euros tengan gratuidad

y me dice que no hemos hecho nada pues no sé usted cómo

hemos trabajado en numerosas iniciativas decretos con el objetivo de favorecer y mejorar la ayuda a los menores aprobando por ejemplo el decreto

de personas extranjeras menores de edad en la comunidad autónoma trabajando realizando estudios por tanto señora garrido ya sé que a usted y a mí nos gustaría que las cosas fueran más rápidas pero la cuestión es que tenemos nos hemos dotado de ese

reglamentismo jurídico que a veces impide avanzar con las velocidad que nos gustaría

es verdad que estamos poniendo en marcha diferentes medidas diferentes medidas concretas con presupuesto encima de la mesa

y está avanzando en las políticas públicas aumentando los presupuestos

que es lo que a todos nos importa eskerrik asko artolazabal andrea garrido andrea zurea da hitza

mire señora consejera si es que no es que lo diga yo que me lo admita no me lo admita que

es la fuerza de los hechos es que aquí es la fuerza de los hechos y los hechos evidencian y corroboran claramente que para ustedes las políticas de apoyo a las familias no es una prioridad o sea fíjese en el balance si es que he hecho un repaso exhaustivo

acabar la vigencia del tercero en el dos mil quince la estrategia que en dos mil quince el lehendakari nos decía que llega en breve

las medidas si es que ustedes llegaron al gobierno en octubre de dos mil dieciséis si tenían que haber estado estos dos años venga a aprobar decretos modificando el decreto de ayudas modificando el decreto de ayudas a las familias con niños a las ayudas a las conciliaciones

señora consejera si tenía que tener los servicios jurídicos del gobierno y del departamento correspondiente colapsados colapsados haciendo decretos

no me venga con excusas porque la responsabilidad es suya

suya y del lehendakari y sobre todo cuando se han incumplido compromisos

anuncios grandilocuentes si quiere brindis al sol porque han sido brindis al sol

cuando este año el presupuesto con esta medida de la excedencia por no decir los incrementos que año tras año en los presupuestos que ha apoyado el partido popular

con las enmiendas del partido popular que además luego ustedes porque precisamente no han hecho los deberes en su tiempo y forma

muy bien la ayuda es la que viene en el programa electoral

del segundo hijo de dos a tres años pero si es que el decreto se ha aprobado este verano

en octubre del dos mil dieciséis señora consejera usted

doce millónes de euros nos dice que en el mejor de los casos se va a aprobar el correspondiente decreto en otoño del dos mil diecinueve y presupuestó diecinueve millónes de euros

no se iba a ver esa medida implantada y encima usted nos anuncia

pero dónde están las políticas de apoyo a las familias las de verdad las que notan las familias vascas que les soluciona la vida que les arregla la vida que les permite conciliar

la situación y el problema estructural que tenemos en relación a la baja natalidad señora consejera

suyos con retraso hasta la fecha muchos incumplidos claro me habla de los países de europa pero si ustedes tenían unos plazos previstos en el plan

de cumplir si la medida estrella una de las medidas estrellas que usted me ha anunciado hoy otra vez aquí me lo

estaba prevista para el año dos mil catorce la ayuda de incrementar de dos a tres años la ayuda por el segundo hijo si estaba prevista para el dos mil catorce y ha llegado en el dos mil dieciocho si ustedes no convergen con europa

les ha dado la gana y porque no han tenido voluntad de hacerlo señora consejera no han tenido una voluntad real de preocuparse por la situación de las familias vascas

es que no no yo no la alcanzo a entender cuatro interpelaciones en cada respuesta

vale evidentemente no solo son ayudas a la conciliación y ayudas para el nacimiento pero usted y usted además ha hecho declaraciones al respecto sabe que estas ayudas por el importe económico que conllevan el presupuesto son muy importantes y por su falta de diligencia las cantidades presupuestarias previstas no se han podido ejecutar señora consejera

pero si es voluntad y considerar este problema como un problema prioritario para este gobierno para el gobierno de las personas que desde luego las familias vascas no están en la agenda política de este gobierno no están y los ciudadanos lo saben y es que ustedes además con todos estos anuncios con estos brindis al sol con estos anuncios que luego se quedan en nada

les dicen cosas que luego no llegan si les están anunciando cosas que no llegan por su propia inacción por la falta de compromiso y por la falta de diligencia

eskerrik asko presidente andrea usted no se cree lo que dice señora garrido de verdad estoy convencida de que no se cree lo que está diciendo de que no tenemos voluntad real de que no queremos apoyar a las familias de que estamos colapsados

correcta y adecuada estamos sacando diferentes iniciativas con el objetivo de sacar y de apoyar a las familias porque me dice desde el año dos mil quince es que señora garrido yo estoy en el año dos mil dieciocho a mí me nombraron consejera a finales de noviembre de dos mil dieciséis empecé a trabajar

tengo un año natural para poder hacer todas las iniciativas políticas que me está usted reclamando y que las hicimos porque el decreto

se han aprobado en este año dos mil dieciocho en el mes de mayo con carácter retroactivo por lo tanto hemos tardado un año que es lo que se tarda en este gobierno para aprobar los decretos le guste o no le guste señora garrido falta de ejecución se lo he dicho en numerosos debates

que usted y yo hemos tenido el número de niños que están naciendo de niños y de niñas que están naciendo en euskadi está disminuyendo y este es un dato objetivo y también cuando hemos estado negociando con ustedes le he dicho que no incrementásemos esas partidas

suficiente número de niños y de niñas y de familias para poder atender me dice que aumente las cuantías o que alargue

incrementando en cuánto a seiscientos usted cree que por doscientos euros más voy a poder mejorar la tasa de natalidad señora garrido creo que nosotros hacemos cuestiones e implementamos políticas más serias

los recortes que se produjeron por una situación de crisis económica muy compleja y que nos obligó a todas las administraciones a ajustar los presupuestos en el año dos mil catorce teníamos cuarenta y siete millónes de presupuesto en ayudas a la conciliación y a los nacimientos

sesenta y nueve millónes y medio y la propuesta que habíamos hecho en el presupuesto

en este tipo de ayudas con lo cual señora garrido no me diga que no hemos revertido los recortes que se produjeron y que no apoyamos a las familias realmente

un mensaje que están intentando trasladar a la sociedad de que este gobierno no confía en las familias que no las está apoyando cuando además lo estamos haciendo de la mano de las asociaciones que trabajan en este ámbito

hemos tenido que realizar esa ciaboga creo que la estamos orientando hacia objetivos y hacia una ruta adecuada y en ese cambio de ciaboga la

que esté con nosotros intentando apoyar de una forma real a las familias vascas

de su interés pero tienen que avanzar ustedes en su discurso señora garrido los presupuestos de la comunidad autónoma que ustedes han rechazado suponían

para la juventud para nuestras personas mayores y para las más vulnerables y para el bienestar en general y son avances en el apoyo a las familias y a la conciliación y a la corresponsabilidad previstos en nuestro proyecto de presupuestos que ustedes no han apoyado

y a la sociedad en general esta situación señora garrido es decepcionante y preocupante pero la sociedad vasca va a tenerlo en cuenta ahora ante esta nueva situación presupuestaria

estima necesarias para la protección y apoyo a las familias y para que se materialicen y no tenga duda que lo vamos a hacer eskerrik asko

sailburuak mahaiburu andrea legebiltzarkideok desde elkarrekin podemos estamos preocupadas por la situación de niños niñas y adolescentes que pueden ver restringido el ejercicio de sus derechos cuando se producen crisis familiares que desembocan en separaciones o divorcios de los progenitores

los derechos de niños niñas y adolescentes deben de ser protegidos por las personas adultas sin embargo seguro que todas hemos conocido situaciones

el cumplimiento de las obligaciones de los progenitores respecto a hijos e hijas se convierten en parte del conflicto y a menudo la conocida como pensión

para quienes no estamos familiarizadas con las palabras que se utilizan en el ámbito comparto que la pensión de alimentos consiste básicamente en la cuantía que se fija a favor de hijos e hijas repito cuantía que se fija a favor de hijos e hijas

ordinarios derivados de su proceso de desarrollo crianza y por consiguiente de ejercicio de sus derechos son todos aquellos gastos previsibles y periódicos necesarios para su manutención incluye alimentación ropa enseres personales educación atención a su salud

generalmente se establece que el progenitor que no asume la custodia de los menores de edad es decir el que no asume la responsabilidad cotidiana de su bienestar el que no convive día a día

y cumpla con su obligación entre otras vías a través de la pensión de alimentos todas ellas son responsabilidades básicas que todas y todos los que decidimos criar hijas e hijos debemos asumir haya o no haya convivencia cotidiana en la misma vivienda

recalco esto último porque quiero aprovechar esta tribuna para subrayar la importancia de poner en el centro el bienestar de hijos e hijas cuando se trata de estas cuestiones

en la calle en medio o en ambientes informales he escuchado cómo se descalifica a la pensión de alimentos se ningunea o se pone en cuestión

es importante que este tipo de confusiones no se extiendan si analizamos las separaciones o divorcios y las custodias que se establecen incorporando la perspectiva de género con los datos desagregados por sexo en primer término nos vamos a encontrar con que con que todavía son las mujeres fundamentalmente quienes asumen las custodias

de las familias la responsabilidad última de cuidar de criar y brindar bienestar a hijos e hijas

de hecho el porcentaje de padres que asumen enteramente la custodia es anecdótica

hay datos que nos indican que afortunadamente de forma progresiva la realidad va cambiando

la custodia conjunta de padres y madres en los casos de divorcios muestra una evolución de muy rápido crecimiento en cuatro años esta modalidad ha pasado del diecisiete coma cinco por ciento al treinta y cuatro coma tres es decir prácticamente se ha duplicado sin duda está directamente vinculado con que

están más presentes y comprometidos con los cuidados cotidianos necesarios para el desarrollo de niños niñas y adolescentes sin embargo pese a esta evolución que nos invita a ser

un sesenta y uno coma cinco por ciento mientras que los casos de custodia en exclusiva de los padres son muy escasos apenas un cuatro coma dos por ciento

la manutención de hijos e hijas suele constar en las sentencias de separación y divorcio cuando es necesario el pago de una pensión alimenticia

disoluciones en las que sí procede el pago de la pensión es más habitual que este atributo

o que este sea atribuido a los padres en el treinta y nueve por ciento de los casos

entre las principales consecuencias que acarrea las separaciones y divorcios se encuentran la reducción o pérdida de ingresos y en la capacidad adquisitiva de la familia en su conjunto y esto impacta especialmente en el nuevo núcleo de convivencia el que está integrado por hijos

adulta que asume la custodia de hecho en algunos casos se pueden ocasionar situaciones de pobreza o riesgo de exclusión social

diversos especialistas en la materia se pueden agravar cuando son las mujeres las que ostentan la custodia de los hijos y lo que como

todavía la circunstancia más frecuente se puede concluir que hay un porcentaje elevado de mujeres que asumen la custodia de hijos e hijas

a este panorama que es más bien generalizado se le añade que en algunos casos la pensión de alimentos se convierte en el caballo de batalla y es significativo el número de progenitores que no cumplen con esa obligación

recaen sobre una sola progenitora sola progenitora

e hijas de manera que aumenta el riesgo de que niñas niños y adolescentes vean mermadas sus oportunidades para el desarrollo y el ejercicio de sus derechos

anual de la fiscalía se puede observar datos representativos de estas situaciones en el caso de bizkaia

en el caso de gipuzkoa en la misma línea cuatrocientos sesenta y cuatro casos

contra relaciones familiares ciento veintiuno fueron por impagos de pensiones como vemos en los tres territorios el impago de

se denominan delitos contra relaciones familiares esos son solo algunos casos que llegan a los juzgados

especialistas coinciden que son muchos más de los que realmente se denuncian por todo esto nuestra preocupación porque los derechos de niños niñas y adolescentes

creemos firmemente que se debe y se puede intervenir para proteger cuando las familias y responsables directos no responden como deben

a solas con el bienestar de hijos e hijas y con procesos familiares y judiciales complejos

qué medidas específicas promueve el gobierno vasco para asegurar el ejercicio de derechos de niños y niñas adolescentes en aquellas situaciones de separación y divorcio

eskerrik asko berriro presidente andrea señora arana nosotros también

y nuestra actuación se enmarca en lo que es el cumplimiento de la normativa existente en aquellas materias en las que somos competentes

o separación de los progenitores nos debemos al cumplimiento de dos leyes por un lado la ley tres barra dos mil cinco de atención y protección

de relaciones familiares en supuesto de separación o ruptura de los progenitores la ley de atención y protección de la infancia y la adolescencia nos ofrece un marco normativo

con la aprobación de esta ley la infancia ha pasado de ser objeto de protección a ser un sujeto de derechos

en este sentido se ha desarrollado desde el gobierno vasco en colaboración con el resto de las instituciones un instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo que se regula

instrumento valora este instrumento que también se utiliza para valorar los riesgos de los menores en situaciones de ruptura de pareja es algo que nos está ayudando sobre todo a las diputaciones y ayuntamientos que son las instituciones que las utilizan

este instrumento ha sido diseñado para ser aplicado como le decía en los servicios sociales municipales y también por los servicios de atención y protección a la infancia y a la adolescencia

para la guarda de los niños y niñas y adolescentes por parte de sus padres madres o personas tutoras y a través del uso de esta herramienta

pueden anticipar e intervenir en situaciones de riesgo de desprotección que son las que se pueden producir cuando los progenitores no cumplen con las obligaciones en caso de separaciones o divorcio ese instrumento

el pasado mes de mayo con el objetivo de mejorarlo y adaptarlo a las nuevas necesidades y situaciones que una de ellas puede ser

la ley de infancia por otro lado tiene como objeto garantizar el ejercicio de derechos

en el que deben ejercerse las actividades de fomento de los derechos y del bienestar de los y las menores además también define los principios de actuación y el marco competencial

en el principio inspirador de la ley de infancia y adolescencia se recoge que las actuaciones públicas que guarden relación directa con la infancia y adolescencia deberán tener como base el interés superior del menor y nuestro deber como institución es trabajar para y por este principio del interés superior de la persona menor

nuestro deber es trabajar para que los y las menores vascas puedan tener igualdad de oportunidades en su desarrollo e integración

entendemos que esta labor de proteger y apoyar a la infancia es responsabilidad de todos los niveles institucionales y también de las distintas áreas del gobierno

está dedicado exclusivamente al bienestar de la infancia y adolescencia también para los casos que se produzcan rupturas o separaciones de los progenitores y que tengan consecuencias en los menores y en cuanto a la segunda ley que le decía la de relaciones familiares

pone a disposición de las familias vascas el servicio de mediación familiar este servicio

matrimonios o parejas de hecho o también por otras circunstancias surgidas en el entorno familiar está disponible en los tres territorios y este servicio

el ochenta y seis coma cinco por ciento de la intervención que se realiza en este servicio se debe a conflictos derivados de rupturas

el setenta y siete por ciento de los expedientes finalizados en dos mil diecisiete en los servicios públicos de mediación familiar se cerraron con un acuerdo sobre la situación planteada originalmente lo que en muchos casos evitó que las personas usuarias del servicio tuvieran que iniciar

y de esta forma se evitaron situaciones de desprotección que se podrían generar si no hubiera acuerdo entre los progenitores en la protección de sus hijos e hijas

y hemos comprobado que transcurrido un año el noventa y cuatro por ciento de las personas usuarias de los servicios de mediación familiar siguen responsabilizándose de sus acuerdos

esto hace que se puedan generar situaciones de desprotección y por tanto se activa

en los casos en que la unidad convivencial con menores a cargo que no dispone de ingresos suficientes y necesite de una renta de garantía de ingresos si existe una denuncia por parte del cónyuge que no recibe la pensión compensatoria puede hacer valer sus derechos y con la denuncia que presente por parte del juzgado

no se computan ya como ingresos y por tanto se le concede la prestación y en aquellos casos en la que

está establecido en el convenio regular lanbide complementa este ingreso hasta las cuantías máximas previstas

como le decía es deber de todos trabajar por garantizar el interés superior del menor en cualquiera de las circunstancias en que se encuentre y en el marco de las competencias que tenemos como gobierno vasco

arana nosotros dentro de nuestras competencias actuamos previamente cuando se produce la ruptura o el conflicto en el ámbito de la mediación familiar y si no existe entre las partes y se produce un incumplimiento del convenio regulador y existe una denuncia que la parte que tiene que percibir esa ayuda no recibe ante la denuncia presentada en los juzgados acuden a lanbide y se les concede directamente
la renta de garantía de ingresos hasta que haya una sentencia en firme eskerrik asko

y como decíamos en la primera intervención si incorporamos la perspectiva de género para analizar estas situaciones tendremos en cuenta

las custodias hablamos de un sector de la población las mujeres que ya de por sí

existe una brecha salarial del veinticuatro coma tres por ciento es decir las mujeres en euskadi

dato por cierto que ha aumentado en dos coma dos puntos con respecto al dos mil nueve y todo esto con un gobierno

que ahondan en la brecha salarial medidas que ustedes mismos tachan como perversas para la mujer y que lo siguen teniendo como pertinentes para la igualdad políticas patriarcales en toda regla muy estilo del pnv señora artolazabal impacta en las mujeres por supuesto porque se reduce de forma importante su capacidad adquisitiva muy autonomía económica su capacidad para conciliar vida familiar y laboral

puede aumentar de forma significativa este tipo de situaciones contribuyen sin duda a engordar los fenómenos conocidos como infantilización y feminización de la pobreza

hay que atacar a las causas de ambos de una manera simultánea el otro día mi compañera tinixara guanche facilitaba algunos datos reveladores algunos de ellos el noventa y cinco coma cuatro de las prestaciones complementarias de monoparentalidad son

son responsables de familias monoparentales según emakunde las mujeres sufren mayor pobreza en cualquiera de sus dimensiones y de un modo especialmente grave cuando son mujeres que encabezan

en torno a casi una cuarta parte de niños y niñas está en una situación de riesgo de pobreza o exclusión social de acuerdo con la definición que hace

con este panorama echamos en falta gestos y pasos más firmes para incorporar de forma clara y concreta el principio de interés superior de niños niñas y adolescentes en las normas reglamentos y procedimientos del sistema de garantía de ingresos

la necesidad de revisar las sanciones cuando se trata de situaciones que involucran a unidades de convivencia en la que hay menores de edad por una cuestión de sentido común y de cumplimiento con las normas de protección de la infancia

las medidas que se impulsan para la corresponsabilidad están orientadas principalmente a la corresponsabilidad de mujeres y hombres dentro de las familias ustedes siempre a que los problemas se solucionen en los hogares y no introducen una mirada más amplia

entera cuando se hacen políticas pensando solo en un modelo familiar heterosexual tradicional y siempre feliz los niños y niñas a cargo de una sola progenitora

a ser cuidados respecto a los que conviven con dos progenitores y las mujeres tienen que asumir en una carrera de fondo y repleta de obstáculos todo lo necesario para el bienestar de hijos

los obstáculos que son las medidas perversas por parte del gobierno

en concreto sobre el tema de las pensiones de alimentación se menciona este párrafo de la ley de igualdad que en su intervención se ha olvidado de mencionar las administraciones públicas vascas

económica derivada de pensiones compensatorias y alimenticias

separación legal divorcio extinción de la pareja de hecho por ruptura o proceso de filiación o de alimentos a tal fin crearán un fondo de garantía

nos gustaría que amplíe formación e información sobre el margen de mejora que tienen

como un mandato en materia de igualdad que está pendiente de ser cumplido

responder a esto señora artolazabal eskerrik asko

bueno yo señora arana comentarle que el estilo del pnv y del gobierno en general

ciudadanía en su conjunto sobre todo a las personas más vulnerables o que en situación de vulnerabilidad se pueden encontrar las ayudas que usted está refiriéndose en cuanto a que consolidan y perpetúan la desigualdad

y es algo que nosotros también tenemos detectado dentro del departamento y creemos que es preciso y necesario dar una vuelta y en eso podemos coincidir pero bueno mientras no tengamos

perfecta preferimos mantenerlas en este momento con el objetivo de seguir ayudando a aquellas personas que pueden tener derecho a las mismas usted

y que perpetuamos las desigualdades que no hacemos todo lo que pudiéramos hacer yo señora arana quisiera centrarme en el cumplimiento de las obligaciones y de los deberes

institución tengo y tenemos de cara al cuidado y a la protección y tenemos que dejar bien claro los diferentes planos institucionales la ley de infancia y adolescencia lo que nos dice es que las diputaciones forales y los ayuntamientos son los que les corresponde la realización de las actuaciones en materia de protección en situación de desprotección grave y desamparo que son

también a las diputaciones y a los ayuntamientos pero en general al gobierno las funciones de sensibilización de la opinión pública y por último sí que es competencia nuestra

de las acciones relativas al servicio de información orientación y elaboración y aprobación de los instrumentos de valoración y los protocolos de aplicación

le he comentado anteriormente nosotros hemos mejorado el instrumento balora es un instrumento importante que las instituciones forales y municipales usan para detectar

en los diferentes ámbitos en los que los menores

puedan estar inmersos pero también desde el departamento de empleo y políticas sociales trabajamos por el bienestar de la infancia y de la adolescencia independientemente de lo que otras instituciones hagan y desde luego señora arana nosotros lo hacemos sin tener en cuenta

a este gobierno de que hagamos políticas patriarcales y hagamos políticas únicamente pensadas en la heterosexualidad de las personas oiga no que nosotros

demostrando con hechos la apuesta decidida de este gobierno por la diversidad en su conjunto porque esta sociedad común en el que todos tenemos cabida tiene diferentes diversidades a las que tenemos que atender y desde luego yo creo que todo es mejorable y yo no voy a decir que no se puedan mejorar y en eso estamos y para eso estamos pero que tenemos en cuenta las diferentes situaciones y diversidades y desde luego las diferentes tipos de familia que en este país se están dando y creo

y que también ustedes en numerosas ocasiones nos han trasladado he reconocido y así además aparece en todas nuestras

además del servicio de mediación nosotros también tenemos y contamos con un servicio que se denomina zeuk esan en el que ese servicio

que detectan situaciones de riesgo para los menores y realizan todo tipo de consultas y teniendo en cuenta que a veces ese desasosiego

que se puede generar en una situación de separación de los progenitores disponemos de esos canales en las que se encuentra la escucha y el apoyo de las familias

de poder tener o de tener que hacer

obligaciones desde el sistema de protección social que en este país tenemos

para que esas situaciones de pobreza infantil que se pudieran dar o de situaciones complejas en el ámbito de la familia por el incumplimiento de uno de los progenitores

entrándonos en este último acuerdo el mismo abarca cuatro ámbitos

el régimen de sustituciones el refuerzo de las plantillas de los centros en función de sus necesidades y las condiciones laborales del personal docente

en él se desarrollan aspectos clave para el sistema educativo y sus profesionales

medidas para reducir la interinidad y estabilidad para el profesorado interino sustituciones desde el primer día en todas las etapas refuerzo de la plantillas docentes en las aulas de tres años en función de ratios

incremento de plantillas en formación profesional para atender a la euskaldunización y a la formación dual asignación de personal administrativo a los centros de infantil y primaria

mejora en licencias y permisos por razones de conciliación familiar o la compatibilidad para completar horario lectivo entre otros saila

se está trabajando sobre distintas propuestas de medidas para reducir la interinidad a través del análisis del modo de provisión de las comisiones de servicios los procesos y concursos de traslados y la actualización de las relaciones de puestos de trabajo

debemos referirnos también a las distintas propuestas contempladas en el anteproyecto de presupuestos de dos mil diecinueve qué decir es indudable que parte de esos acuerdos que deben tener su reflejo presupuestario como en distintas ocasiones ustedes nos han reconocido pues bien ustedes han decidido no respaldarlo

pedimos corresponsabilidad colaboración implicación llegamos a acuerdos con los agentes sociales y ya tenemos su respuesta y colaboración zalantzarik gabe akordio horietako batzuk

una decisión que como administración responsable nos corresponde adoptar y ante un problema concreto hemos dado una solución un imprevisto un problema imprevisto

una solución que pasa por mantener a todos los alumnos en un mismo centro y para ello la única opción era artazu goikoa y ahora estamos trabajando en habilitar el edificio de minas
para que los alumnos de trueba puedan volver a barakaldo lo antes posible eskerrik asko

y los diferentes ministerios del gobierno del estado existen convocatorias financiadas por otras entidades y asociaciones sin ánimo de lucro museo del prado

diputación foral de gipuzkoa entre otros muchos por ello y en respuesta a su pregunta la retribución fijada en dichas convocatorias en todas ellas incluidas las del departamento varía
en función de la modalidad el tipo de convocatoria y sobre todo la dedicación eskerrik asko

las retribuciones no dependen del programa las retribuciones dependen de la ley de ciencia tecnología e innovación su artículo veintidós dice que la retribución de los contratos

que realice actividades análogas es decir el personal investigador que tiene becas

usted ha hablado de excelencia yo le voy a poner un ejemplo de excelencia tenemos un doctorado

con mención internacional viene del estado ha tenido estancias de investigación en reino unido y en estados unidos ha tenido varias publicaciones de impacto a nivel internacional

una era irse a latinoamérica con un contrato para dirigir un proyecto de investigación y la otra era conseguir una beca

coge la segunda vía usted cuánto pagaría como responsable de ciencia e investigación por una persona de este tipo en la upv por un investigador postdoctoral se pagan treinta y tres mil euros esta persona cobra veintiuno mil quinientos

euros es lo que paga la excelencia la upv

euros en doce pagas esto por ejemplo para vivir en una población como donostia y apostar por la upv y además

atrae un proyecto de investigación de varios miles de euros a la universidad del país vasco

y yo me pregunto a la upv le sobran investigadores de esta talla la upv está en el ranking

en el ranking estatal está la cuarenta y uno de sesenta y uno en innovación y desarrollo tecnológico

no podemos complementarnos a lo que dice la ley que es que cobren lo mismo que el personal investigador de la upv dónde está la diferencia en que hayan

una beca estatal mire las becas juan de la cierva y las ramón y cajal son las becas

las de más prestigio con diferencia se presentan cada año

les ha dicho no haber firmado el contrato a usted le parece que esto es una respuesta

de una universidad pública que está apostando por la ciencia y la tecnología yo lo que le digo es complementar los sueldos de estas personas

no más en esto es en lo que valoramos la excelencia realmente en la upv en que complementar a estas veinte personas nos llevaría eso es la décima parte

y yo lo que le pido es que por esa cantidad de dinero
les hagan un regalo de navidad que no sería un regalo sería un reconocimiento a su meritoria labor gracias eskerrik asko becerra jauna

lortutako eskarmentuan oinarrituta quién establece el sueldo adicionalmente se debe recordar el papel fundamental de la comisión de investigación desarrollo e innovación

con el objeto de impulsar y coordinar el esfuerzo investigador de la comunidad universitaria a través de la planificación análisis y evaluación de la misma dirigidos a la estructuración

dicha comisión asiste al consejo de gobierno de la universidad en la planificación coordinación estímulo

y elabora propuestas sobre la política general de investigación y sobre las prioridades de actuación es el marco de esta comisión en el cual se deben plantear en el caso de que se considere oportuno cualquier propuesta o medida de adecuación en relación a la política retributiva del personal investigador

lo que está sucediendo en algunas facultades de la universidad del país vasco es una auténtica vergüenza y lo que sucedió hace poco más de quince días es un escándalo inaceptable que un grupo de cafres encapuchados persiguiera buscara

acabara apaleando a un joven estudiante de la universidad del país vasco por supuesto que además de no tener la más mínima justificación reclama una respuesta urgente y contundente del gobierno al que usted pertenece y singularmente de usted usted tiene el poder político

para tomar decisiones y corregir esta deriva preocupante que empieza y que continúa propagándose por la universidad del país vasco donde la ley del más fuerte del más radical

a través de esta pregunta señora consejera quiero conocer una respuesta muy clara qué va a hacer usted con el poder político que tiene para que esto no vuelva a suceder eskerrik asko

señor sémper me gustaría iniciar mi intervención reiterando mi más absoluta condena y rechazo a la brutal agresión sufrida por el alumno de la facultad de letras de la upv

el pasado día treinta de noviembre en las inmediaciones del campus universitario de álava asimismo quiero expresar mi total apoyo al estudiante y solidarizarme con su familia y su entorno académico también deseo trasladar mi respaldo a la universidad del país vasco

kasua en estos días de celebración de aniversario de la universidad de bilbao

instituciones alumnado y el esfuerzo que supuso la creación de una universidad del país vasco no puedo más que manifestar y defender

el pasado día cinco de diciembre la universidad del país vasco emitió un comunicado de condena expresa

junto al comunicado con el objetivo de manifestar el más absoluto rechazo a esta agresión

convocó a toda la comunidad universitaria a una concentración el pasado lunes diez de diciembre en la puerta principal de la facultad de letras

soy participe de la preocupación de la upv ehu ante este tipo de acciones y todas ellas que puedan vulnerar los derechos fundamentales de las personas

y respeto dentro de como les corresponde su autonomía universitaria ante la cual además de mantener una coordinación les manifiesto en estos momentos nuestro respaldo

las palabras las concentraciones los gestos de rechazo

pero son insuficientes lo que se espera de un gobernante lo que se debería de esperar de alguien que tiene como le he dicho antes responsabilidades políticas de primer orden en una materia es que tome decisiones que haga algo para corregir algo que no funciona y le vuelvo a insistir tiene que ser usted consciente de la dimensión de lo que estamos hablando

la universidad del país vasco permite espacios a grupos intolerantes se les ceden locales se permite la colocación indiscriminada de pancartas que jalean a una organización terrorista se permiten homenajes y se celebran homenajes

a un terrorista y también le pregunté qué iba a hacer usted para corregirlo no solo no han hecho nada sino que de aquellos polvos vienen estos lodos señora consejera tiene que ser usted

en un espacio que es el espacio de la palabra y de la confrontación libre de ideas claro que sí pero es que además tiene que ser usted consciente de que a esa vulneración de la libertad

que no es capaz de aparecer en ningún ranking internacional como una de las universidades más punteras y que esto lejos de favorecerla la perjudica notablemente señora consejera

y ante un problema de prestigio universitario y las dos cosas si no se actúa se acrecientan

qué sucedería en este país y esto es una pregunta que hago a todos qué sucedería en este país si en la universidad pública del país vasco conociéramos que permite por ejemplo

a un grupo que habla y que defiende la superioridad de la raza blanca nos parecería un escándalo como es natural qué sucedería sí quince energúmenos encapuchados hubieran perseguido a un gay y lo hubieran apaleado en la universidad

drásticas y contundentes pero no era un chaval es un chico es un colectivo es un grupo humano que defiende

y esto quizás a algunos no les obliga a reaccionar con contundencia

en la universidad señora consejera actué haga algo no venga aquí a decirnos solo palabras bonitas venga a decirme qué va a hacer

sabe perfectamente cuál es la capacidad de acción que tiene el gobierno en la universidad del país vasco

adoptando medidas va adoptando medidas tiene protocolos recientemente ha probado un nuevo reglamento se han abierto los espacios no pueden ser espacios cerrados señor usted

para tener unos réditos políticos en estos momentos no todo vale no todo vale no se puede utilizar a la universidad

semilla de debate progreso y consenso para atacarlo por unos intereses partidistas está muy fuera de lugar las medidas se van tomando sea un grupo u otro siempre que haya vulneración de derechos

se han producido algunas detenciones y veremos cuál es el recorrido judicial pero por favor no nos lleve a conjeturas interesadas y partidistas ganbara honetan beste hainbat kasutan esan dugun bezala

consejero compañeros y compañeras parlamentarias estábamos contentos porque se iba a regular la participación ciudadana en los centros de salud

a la expectativa y efectivamente saco el boletín oficial del país vasco del once de julio

con criterios de comunicación transparencia y participación lo leímos despacio

y observábamos que participación ciudadana empoderamiento ciudadano participación de la gente eran funciones de la dirección

de las osi de la dirección de atención integrada de la dirección de enfermería los artículos ocho once y doce y fuimos a los órganos de participación quitando el consejo sociosanitario hay dos órganos de participación

y el consejo social artículo veintiuno cuya composición plantea que de catorce miembros tres vocales serán de organizaciones comunitarias o empresas del ámbito geográfico de la osi y se reunirá

nos quedamos francamente sorprendidos el señor consejero no piensa establecer impulsar potenciar o desarrollar la participación ciudadana directa
de las personas en los centros de salud eskerrik asko uria jauna

irmoa dute el compromiso del departamento de salud y de osakidetza con las personas y con la participación ciudadana es firme está

como usted bien sabe de hecho la participación ciudadana es uno de los principios rectores del sistema sanitario de euskadi

junto a los principios de universalidad solidaridad equidad y calidad de servicio todos ellos presentes desde entonces en cada plan o línea estratégica definida

eficiente y moderna donde la participación ciudadana tenga una mayor presencia así como usted ha reconocido se refleja explícitamente en el decreto cien barra dos mil dieciocho de tres de julio de las organizaciones sanitarias integradas

hace escasos meses beraz zure galderari erantzunez

dekretua hain zuzen ere el decreto que como usted conoce fue como todos los decretos a exposición pública recoge todos los planteamientos que en el ámbito de participación ciudadana usted nos hizo exactamente ninguno eskerrik asko

compañeros y compañeras efectivamente de los cuatrocientos centros de salud que existen aproximadamente en osakidetza en ninguno hay participación

usted lo sabe consta en todos los documentos sobre estrategia

hay consenso sobre el tema aquí no se trata de quién hace el discurso más hábil señor consejero está todo dicho el documento

recomendaciones del consejo asesor sobre el buen gobierno de la sanidad pública vasca

en el libro blanco sobre democracia y participación ciudadana dos mil catorce en la guía para el impulso de la participación ciudadana

no es un problema que estemos en desacuerdo en las palabras consta en todos los documentos usted lo ha explicado bien nos estamos refiriendo a la participación

a estar informada a participar en la gestión a participar en el proceso de toma de decisiones y en los procesos de evaluación de la calidad y funcionamiento del centro de salud al fin y al cabo la participación social es estar dispuesto a compartir poder que es el quid de la cuestión de eso estamos hablando

las quejas reclamaciones sugerencias las propuestas

no agotan los procesos están bien pero no nos confundamos

está bien no nos confundamos eso es para autogestión en salud está bien la osasun sarea

no es participación en la gestión de los centros entiendo que tiene usted unos cuantos problemas pero debemos todos reflexionar sobre qué es lo importante

en nuestros puestos de trabajo porque no es lo mismo eskerrik asko eskerrik asko uria jauna darpón jauna zurea da hitza

estructura la participación ciudadana como base central de las organizaciones

los hospitales y los centros de salud incluye de forma explícita la participación ciudadana como un ámbito de atención por sus órganos directivos y a la vez estructura y promueve sus órganos de participación horrela lehenengoz osakidetza

gizarte kontseilua eta batzorde sozio sanitarioa se crea un consejo social que incorpora la visión de representantes del ámbito municipal foral del ámbito comunitario económico y social del territorio de cada organización sanitaria

este consejo social asesora a la organización y propone mejoras en materias sociales y comunitarias es decir participación ciudadana real

son las comisiones socio sanitarias un órgano de asesoramiento y participación compuesto por profesionales de la propia osi

de la farmacia comunitaria de los ayuntamientos y de las áreas sociales de las diputaciones correspondientes ikus dezakezunez uria jauna parte hartzearen

laguntzen gaituela la participación ciudadana nos preocupa de hecho hemos incluido órganos nuevos en el decreto que no existían

en una reciente comparecencia el consejero de cultura anunció que el instituto etxepare va a realizar un programa de actividades en escocia en dos mil diecinueve o sea escocia dos mil diecinueve sede o

etxepare va a desarrollar sus funciones de una manera prioritaria con un programa especial en relación con lo que

cuál es la razón que lleva a su departamento a priorizar escocia como objetivo cultural del gobierno vasco en este caso a través

etxepare no hay quizá más capacidad y posibilidades de influencia

en algunas otras partes del mundo tenemos interés en la respuesta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zupiria jauna zurea da hitza

ya nos lo ha dicho o sea una estrategia a través de un instituto

una estrategia más política que cultural esa estrategia del gobierno vasco en el que ha elegido algunas regiones por unas características coincidentes con la ideología política del gobierno

en este caso priorizadas a la hora de establecer y además referencias

en muchas partes del mundo y además más ligados a la presencia vasca no nos cabe ninguna duda no sé

la memoria dos mil diecisiete que es la última que ha llegado del instituto etxepare

actividad en otras partes del mundo a través de cátedras con universidades incluso en el programa artístico y cultural ha habido con otras referencias

un programa especial dos mil diecinueve con escocia no solamente tiene que haber una obligación política que se canaliza además

cuáles son su fines promover la enseñanza y el uso del euskera cultura vasca donde haya presencia vasca

es que en escocia no hay ni una euskal etxea

ciento noventa y tres ustedes aprobaron las dos últimas en el pasado consejo

tampoco hay ninguna cátedra de universidad hay un lectorado que tampoco lo hemos visto que ha funcionado durante los últimos años de una manera efectiva en la universidad de edimburgo pero

que compagina la actividad con el instituto etxepare en muchos otros sitios no ha habido actividad cultural es que vea

es decir entendemos que aquí hay un planteamiento político no justificado en el tiempo

pero es que hay en francia muchas hay en italia hay

en uruguay en brasil en chile en estados unidos no digamos no en fin escocia que no tiene apenas presencia vasca va a ser
de un programa especial del instituto etxepare porque bueno porque escocia nos gusta políticamente muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

presidente andrea barrio jauna ya me di cuenta en cuanto pronuncié el nombre escocia en la presentación de presupuestos que se puso usted cachondo

esta pregunta el año dos mil diecisiete tanto por el impulso de etxepare como por los convenios

convocatorias que tenemos destinadas a la internacionalización de la cultura vasca como habrá podido usted comprobar en la memoria de dos mil diecisiete hubo representación vasca en muchas ciudades del estado español en francia bélgica polonia grecia italia alemania reino unido croacia ucrania estados unidos méxico cuba portugal costa rica uruguay italia argentina países bajos colombia suecia dinamarca

la reciente gira que ha realizado la orquesta sinfónica de euskadi a alemania y austria son elementos de la proyección internacional de la cultura vasca en los ámbitos de la literatura la música las danzas y artes escénicas

sin restar nada a ninguno de estos proyectos de cara al año dos mil diecinueve escocia es una iniciativa que sumamos a esta proyección internacional y por qué escocia escocia es un territorio con el que existen intensas relaciones en ámbitos tan dispares como el institucional el económico

el turístico no sé por qué no le ha hecho esta pregunta a mi compañera arantxa tapia preguntando por qué iberdrola está en escocia creo que se la debería hacer

la estrategia basque country identifica diferentes regiones en europa

relaciones especiales y promover la internacionalización los festivales internacionales de escocia no son solo una plataforma interesante para presentar

a los creadores vascos sino que son un lugar estratégico señor barrio para la internacionalización de artistas y empresas culturales por la gran repercusión que tienen esos festivales en todo el mundo

son festivales que reúnen a distribuidores y programadores internacionales y por lo tanto

especial y se propone etxepare crear unas ventanas especiales unas ventanas vascas con el objetivo de dar a conocer la lengua y la cultura vasca en escocia y a través de sus festivales en todo el mundo y para ello está prevista la presencia de creaciones vascas en los siguientes festivales

y de contenido académico en las universidades de edimburgo glasgow y y no es suficiente querer estar

gracias señora presidenta buenas tardes ya a todos señora consejera

como pedro por su casa organizaciones y personas que no respetan los derechos fundamentales

que persiguen con la misma cobardía que les ha caracterizado siempre y que empapelan las paredes de la universidad con amenazas esto sigue ocurriendo en nuestra universidad

existe y la estamos padeciendo mejor dicho la seguimos padeciendo

incidentes que ha habido últimamente en la upv individuos que actúan con comodidad impunidad con la misma chulería de siempre sabedores de que no les va a ocurrir nada y con esa misma impunidad hace dos semanas apalearon a un joven vitoriano y lo mandaron

lo apalearon por defender la libertad por poder pensar como quisiera y luego celebraron su hazaña fascista

porque siguen campando elementos nostálgicos de ese pasado terrorista y fundamentalista siguen actuando los nostálgicos de eta del terrorismo del fascismo y del totalitarismo y bien cerca de este parlamento en la universidad en la institución que debía de ser

porque parece que algunos se dedican a seguir matoneando

que más allá de las condenas y del repudio que seguro que usted lo siente y que seguro que lo va a volver a decir hoy aquí más allá de eso le pido que me conteste con hechos le pido que nos explique en este parlamento si considera normal que la ertzaintza haya tardado dos semanas

que nos explique si tiene como dice la ertzaintza identificado desde hace tiempo

a unas personas vinculadas con la izquierda abertzale y vinculadas con ese pasado

permanece por qué no hace nada por qué no ha hecho nada y ha permitido que haya ocurrido lo que ha ocurrido hace quince días eskerrik asko

efectivamente usted lo ha dicho y por desgracia agresiones violentas de este tipo de las que hemos visto en la universidad del país vasco el pasado día treinta aquí en gasteiz la seguimos viendo

ejercicio permanente de la convivencia por la que la mayoría apostamos se producen además desde postulados radicales del color que sean se siguen produciendo e independientemente de qué postulado sean la violencia es condenable desde todos los puntos vista se produzca donde se produzca y se produzca bajo el criterio

y evidentemente como usted bien lo ha señalado siempre tendrá toda nuestra reprobación pero independientemente de esto la ertzaintza qué hace me pregunta usted pues investiga persigue

las labores necesarias para tomar las pruebas que incriminen a los causantes de cualquier delito la ertzaintza ha actuado también en esta ocasión me preguntaba usted a la hora de formular su pregunta por qué no había detenido a nadie la ertzaintza todavía cuando se han producido las detenciones

mire las investigaciones policiales no son sencillas lo hemos dicho más de una vez

tomar pruebas que incriminen a los causantes de cualquier delito y en eso trabaja la

y en la recogida de testimonios inmediatamente que recibió la primera llamada a través del

esta agresión esta brutal agresión a partir de ahí el trabajo de investigación ha seguido el trabajo de investigación ha dado los primeros frutos con esas tres personas detenidas

con cargos y con la obligación de mantener una distancia al campus y la investigación sigue abierta señora llanos eskerrik asko beltrán de heredia andrea

tenemos la sensación de que hechos como los ocurridos hace dos semanas en la upv tratan de pasarlos

y que no se actúa con la determinación que merecen hechos de tanta gravedad

ante actos intolerantes que no denuncian que callan que optan por mirar para otro lado mientras estos grupos

a diario las facultades de la universidad vasca para hacer propaganda de su ideología fascista y totalitaria y por eso precisamente estos matones hicieron lo que hicieron porque se sienten impunes porque perciben amparo para poder hacer lo que les da la gana lo ocurrido

es muy grave porque es un síntoma porque pone de manifiesto que la violencia sigue estando presente en algunos espacios de la sociedad vasca y las instituciones la upv desde educación y ustedes de la ertzaintza

porque sí pasa a usted le parece normal que fuera la guardia civil la que tuviera que actuar ante los homenajes en la universidad qué pasa que la ertzaintza no lo sabía qué pasa que lo sabía pero que no podía actuar

ninguna duda y por eso me cuesta creer que hayan tardado dos semanas dos semanas en detener solamente a dos

absolutamente violenta de esos estudiantes o no estudiantes de la universidad del país vasco no hayan hecho nada y hayan permitido que haya pasado

cuál ha sido la actuación de la ertzaintza en este caso y en otros casos

y al margen de valoraciones políticas o personales sobre la ideología de quienes participaron

la sensación como dice usted de que se pasa por alto dejar entrever ciertas

no defiende la libertad y los derechos de todas las personas me parece que tiene que es grave

profesionales cuando previamente ha dicho que dejan pasar por alto

de delitos y además da la sensación de que usted o el grupo no sé tiene fuentes informantes que parecen tenerlo todo muy claro siempre muy claro una cosa son las sospechas y otra cosa son las pruebas que incriminan y otra cosa son las pruebas que demuestran que alguien ha participado en una acción que ha cometido un delito entre la sospecha y el indicio y la prueba que vincula a las personas con un delito

se trata siempre de que los culpables sean quienes fueren con todas las pruebas que les incriminen con todas las pruebas que argumenten y basen esa

y además bueno obtengan la condena y el castigo merecido y en este caso

suficiente y además tampoco le parece convincente y además

en este caso las investigaciones como le digo han dado sus frutos ahí están

con el mismo rigor y con la defensa y el cumplimiento de las normas y las leyes que todo estado de derecho nos ha otorgado ahora y siempre